hoy también estamos hablando de vidas precarias porque los proyectos de vida de las personas jóvenes

estas vidas no se pueden sostener si las instituciones no cumplen su deber

la precariedad laboral no es más que otra consecuencia terrible de las malas decisiones de la pésima gestión y hoy es justamente eso lo que estamos viendo que de aquellos fangos estos lodos que haber puesto al capital y a los jauntxos de confebask a la cabeza de las políticas públicas supone precariedad

handienetarikoa dugula europan ere últimamente abrimos portadas de periódicos y los titulares del teleberri con el

la pobre chavalería que no tiene trabajos decente pobrecitas pero aparte de reconocer

desde vuestra posición no se hace nada y lo diremos siempre porque me parece lo básico en política estas sillas y estas posiciones de poder no se pueden utilizar para seguir

se están convirtiendo estas prácticas y saben ustedes por qué pasa esto porque nadie los limita son totalmente legales y muchísimas empresas usan estos mecanismos porque la mano de obra barata de la gente joven

es más reciben además incentivos por ello es decir podríamos decir que la explotación de los jóvenes es práctica habitual en las tres provincias

iruditzen zait prekarietateaz aritzen zaretenean diskurtso interesatuak entzun behar izaten ditugula hemen porque claro cuando todo el mundo habla de precariedad

hablando de la inestabilidad en el empleo de los jóvenes os habéis tenido que subir al carro porque es imposible no hablar de ello

agertu eta desagertzen den zerbait erantzuleak existitzen direla asumitu gabe y señores y señoras a las cosas por su nombre y a los problemas

de la precariedad laboral juvenil desde luego en opinión de nuestro grupo

un problema que llegue con la pandemia es más creemos que es un problema estructural que vive este país

juvenil desde hace muchos años se vino convirtiendo en una pieza clave del modelo económico en este estado

de alguna manera se consiguió que la juventud pasase a engrosar el ejército de

que permita un modelo económico basado en salarios

y en condiciones de trabajo precarias y de ahí los dos elementos fundamentales que han venido caracterizando a

altas tasas de desempleo y precariedad en las condiciones de trabajo es verdad que la pandemia ha disparado en los últimos meses

aquí en euskadi hemos visto un repunte importante pero desde luego la precariedad laboral juvenil

viejo es un problema que viene desde hace muchas décadas y que como decía es estructural junto a la precariedad

por encima del cuarenta y dos por ciento es decir casi la mitad de las personas jóvenes quieren trabajar y no pueden pero como decía esto solo viene a agravar una penosa situación

muchos años la situación viene empeorando desde que se comenzaron a aprobar reformas liberales allá

y que supusieron entre otras cosas un aumento sin retorno de la temporalidad que en el caso de la juventud es algo omnipresente por eso a nuestro grupo nos gustaría contextualizar brevemente el asunto que se trae hoy a debate

que la huelga más potente que hemos vivido en el estado español fue precisamente la del catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho convocada

del entonces gobierno de felipe gonzález de aprobar precisamente lo que se llamaba un plan de empleo juvenil destinado a avanzar en la liberalización radical en el mercado de trabajo

el foco en la juventud trabajadora la rebaja de las condiciones y derechos en el trabajo con la excusa de facilitar la contratación de las personas jóvenes

en el tiempo flexibilizar para permitir

de que eso va a traer una mayor contratación algo que a estas alturas de la historia se ha demostrado absolutamente

aquella huelga general la más contundente que ha vivido este país y que seguramente muchas de ustedes tengan en la memoria

fue una gran victoria de las y los trabajadores que obligó a retirar aquel plan

muchas de aquellas políticas se han ido aprobando y aplicando a través de distintas reformas que nos han traído al momento actual pero fue una gran victoria porque ante una engañifa que lleva por nombre empleo juvenil porque las palabras lo aguantan todo

de toda la clase trabajadora en su conjunto después vinieron las empresas de trabajo temporal convirtiendo a las jóvenes y a los jóvenes en temporeros en jornaleros precarios de cualquier sector y oficio yo lo recuerdo muy bien porque a mí me pilló joven en aquella época en la que una semana estabas trabajando de reponedor en alcampo a la semana siguiente estabas paletizando

y a la semana siguiente estabas tintando pomos en una fábrica temporalidad parcialidad y salarios de miseria

la reforma laboral del partido popular además la juventud no ha vivido estos últimos años ninguna recuperación económica

el precio medio del alquiler la opción más asequible para poder independizarse y empezar un proyecto de vida les obliga a destinar más del ochenta por ciento del sueldo solo al pago de la vivienda y a pesar de todo ello y hay que reconocerlo han estado como el conjunto de la clase trabajadora en primera línea durante esta pandemia en algunos

muy específicos además cajeras reponedores repartidores de comida o paquetería que han tenido un papel fundamental durante las etapas de confinamiento la mayoría de las personas jóvenes contratadas durante la pandemia lo han sido con contratos temporales o a jornada parcial

el empleo ofertado para los jóvenes se caracteriza por contratos temporales precarios en los que no se tiene seguro durante todas las horas con jornadas laborales interminables y en los que realizan horas extras que generalmente no son remuneradas y cuando lo son

sin cotizar sin declarar una de las máximas expresiones de esta precariedad

pero que ha afectado de una manera muy especial a la juventud los famosos

pues parece que finalmente se le va a empezar a poner cierto coto

revertir la historia legislativa de las últimas décadas empezando por la reforma laboral del partido popular pero también avanzar en una

o no son empleos pero el gobierno vasco también tiene algo que decir en esto

precariedad laboral requiere también que las políticas para el fomento del empleo no acaben siendo políticas para el fomento del empleo precario

esta afirmación en diferentes debates en esta cámara por parte de nuestro grupo el gobierno vasco dispone de varias herramientas destinadas a fomentar el empleo

pero los requisitos que se plantean en esas herramientas no garantizan que sean empleos de calidad y por lo tanto deberían ser mejoradas si pretendemos que el dinero público que se utiliza vaya destinado a empleo de calidad y no a generar cualquier empleo garantizar salarios dignos de al menos mil doscientos euros debería ser un objetivo y un requisito

hay que hacer cambios hay que hacer cambios para que con dinero público no se perpetúe la práctica de la temporalidad como forma de contratación y junto a ello la precariedad y desde luego

absolutamente ilegales y esto es una práctica muy común también en los empleos subvencionados por programas de fomento del empleo juvenil los programas estos programas no están teniendo ni de lejos

pero además no están garantizando la calidad de los empleos que fomentan

nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de una inspección de trabajo potente donde los expedientes no se acumulen en torres de carpetas ante la cantidad de carga de trabajo una inspección que tenga mayor capacidad para actuar más allá de las denuncias que se presentan

y de manera diría más aguda cuando estamos hablando de la juventud trabajadora no son denunciadas el miedo sigue siendo el mejor aliado de la precariedad

en un sistema capitalista donde lo que prima es el beneficio por encima de todo no es tarea fácil

venden lo que tienen su fuerza de trabajo y las condiciones no las marcan ellos por eso necesitan la protección de las políticas públicas que vayan

a poner coto a esa precariedad junto a los convenios colectivos y la legislación laboral las políticas para el empleo deben tener una línea roja el empleo

en estos momentos estamos muy lejos de poder garantizar eso detrás de los recursos públicos hay mucho empleo precario entre la juventud y eso no es aceptable

la legislación tenemos que cambiarla radicalmente con el respaldo de los sindicatos y la clase trabajadora pero también desde este parlamento tenemos que garantizar dos cosas en nuestra opinión primero el dinero público solo para empleo de calidad y no para subvencionar contraten barato y segundo la capacidad real de controlar que el mercado de trabajo deje de ser

la realidad del desempleo juvenil en todas las comunidades autónomas y en el conjunto de españa sin duda es muy preocupante pero a nosotros

este grupo la coalición partido popular ciudadanos sí nos preocupó un dato que conocimos a finales de año en relación a los datos de la comunidad autónoma del país vasco

un mayor aumento en el tercer trimestre por encima de la estatal en las tasas de desempleo situándose por encima del cuarenta y dos por ciento disparándose doce puntos en el último año

que en el resto de comunidades autónomas que la tasa de desempleo se situaba en el cuarenta coma cuarenta y cinco por ciento en ese sentido al finalizar el año euskadi era la cuarta región con el índice más elevado superado solo por canarias andalucía

creo que sin duda la situación que atraviesan los jóvenes derivada de la pandemia y de la crisis sanitaria y en consecuencia luego la crisis económica y social repercute sin duda en el colectivo juvenil pero sí que es cierto que

escenario generalizado creo que también en el país vasco y teniendo en cuenta que la tasa de desempleo juvenil finalizado el año era un punto y pico superior a la media estatal nos lleva a tener que hacer una reflexión específica también en euskadi teniendo en cuenta además que cuatro de cada diez jóvenes se encuentran en situación

elementos suficientes de aproximación con los partidos que apoyan al gobierno para haber podido lograr un acuerdo en este asunto no ha sido así y bueno pues otra vez

de coincidencia pero con otros aspectos que se señalan en la propuesta inicial no tenemos

de acuerdo porque creemos que también además se incide claramente en ámbitos de la negociación colectiva sí me parece buena la propuesta inicial de elaborar planes de choque que nosotros también lo hemos recogido

a la enmienda de totalidad presentada por el grupo elkarrekin podemos en definitiva

nuestra enmienda que creo que es además bastante sensata y ya digo que creo que el gobierno los grupos que apoyan al gobierno

mejorar la empleabilidad de los jóvenes desempleados especialmente también los que están en situación de precariedad laboral instamos al gobierno vasco a la vez a elaborar y poner en marcha nuevos planes de choque que establezcan unas medidas para hacer frente a la delicada situación

y dado que además está en este debate la vicelehendakari consejera de empleo que creo que hay que hacer una reflexión en relación a lanbide el servicio vasco de empleo

pero obviamente y a tenor de los datos y la realidad necesitamos una transformación del servicio vasco de empleo todo lo que tiene que ver con la intermediación con la orientación con la formación no se han cumplido las expectativas y tenemos que señalar que lanbide es una herramienta fundamental en este momento

de la empleabilidad y sobre todo tiene que ser una herramienta eficaz y un servicio de referencia en este caso también para los jóvenes

el empeño señor lehendakari en esta legislatura creo que fue la gran asignatura pendiente de la legislatura anterior

los deberes y esperemos que esta legislatura se aborde esta cuestión con la prioridad y el rigor que se merece besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

eskerrik asko señora presidenta oyéndola señora

sino propuestas para solucionar el empleo en general y también los problemas de la precariedad

la última de ayer mismo el programa reactívate para que los jóvenes accedan a una oportunidad y además con derechos que no es poco para seguir aprendiendo y en vez de pagar por ello tener ingresos y cotización esto no es que lo proponga la vicelehendakari es que lo contó en primera persona una joven de veintitrés años

ustedes dicen pero también escucho lo que otros dicen eso lo aprendí como secretario general de las juventudes socialistas de euskadi

distintos de nosotros y que tienen experiencias distintas de las nuestras pero mire si quiere vamos a empezar por el diagnóstico la precariedad en el empleo juvenil

ha demostrado con más crudeza en este año covid el desempleo entre menores de treinta años se ha incrementado un veinte por ciento un veinticuatro por ciento si nos referimos a los menores de veinticuatro años

buscando empleo sin encontrarlo pero si nos fijamos en los últimos meses este colectivo es el que con más intensidad se está reincorporando al mercado laboral

menos y este dato tiene una clara explicación que también afecta a otros segmentos de población las personas más afectadas por el vaivén del mercado laboral

por su inestabilidad laboral y en ese sector están los jóvenes pero el mismo dato preocupante nos lleva a otro que también tenemos que darnos cuenta

de impulsar nuevos proyectos en relación a la juventud y el empleo tenemos un gran reto por delante que las nuevas oportunidades que nos va a ofrecer la economía lleguen a los jóvenes en esta legislatura y para eso este gobierno ha asumido el compromiso de poner encima de la mesa las herramientas para conseguirlo el departamento de trabajo y empleo dirigido por la vicelehendakari idoia mendia tiene la vocación decidida

para conseguir no solo reducir las tasas de desempleo sino para buscar que ese empleo sea de calidad y una de las condiciones básicas para la calidad es la estabilidad y ese es el gran talón de aquiles que tenemos con el desempleo juvenil el gobierno vasco ha diseñado una hoja de ruta clara

ayer mismo se reunieron los miembros del consejo rector de la estrategia

una estrategia que cuenta con medidas concretas para las personas jóvenes sí como un plan de choque pero que también

de tratar de confrontar sus necesidades con las que tienen por ejemplo los mayores de cuarenta y cinco años porque el objetivo de la creación de empleo decente con salarios dignos con derechos laborales debe ser el eje transversal para todas las políticas de empleo pero todo esto ya lo saben lo saben porque se lo hemos dicho en las respuestas que han recibido del gobierno lo saben porque se lo dijo la vicelehendakari cuando usted la interpeló precisamente para hablar de la precariedad laboral y también son conscientes de que esto no es una mera declaración de intenciones porque esos compromisos se han cuantificado y por ejemplo el plan de choque de empleo juvenil

para esta legislatura por eso porque ya saben que este gobierno se ha puesto manos a la obra con compromisos concretos y con vocación de sumar me llama la atención

a eh bildu para llegar a un acuerdo en esta materia siempre siempre siempre me haya encontrado con un no un no a intentar acordar

no se puede venir aquí a echar un mitin como el que usted nos ha echado y decir que estas sillas no pueden servir para hacer que la precariedad laboral siga instaurándose

cuando ustedes son incapaces de intentar llegar a un acuerdo para intentar evitar que eso sea así se puede venir para soltar mítines a este parlamento sin vocación de acuerdos nosotros entendemos que no y me da pena porque otros grupos podemos por ejemplo y también el partido popular nos había mostrado su voluntad de explorar un acuerdo y yo creo que había mimbres siempre que quieran verse otra cosa señora de eh bildu es que el objetivo sea otro como por ejemplo buscar el desencuentro

coincidimos en el diagnóstico coincidimos en muchas de las actuaciones de desarrollar pero lo cierto es que cuando planteamos una propuesta de acuerdo

y se lo voy a decir claramente creo que su preocupación por esta materia es tan sincera como la que pueda tener mi grupo y este gobierno pero echo de menos un ejercicio de realidad de bajar a la arena y vencer el vértigo de lograr acuerdos

para que acordemos las políticas de empleo que están en nuestras manos en manos del gobierno vasco e incluso les hemos apelado a que se impliquen también en otros ámbitos donde pueden influir por ejemplo en un nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo veintiuno

y podemos generar ocasiones para el empleo juvenil pero solo conseguiremos que sea de calidad si conseguimos implicar a todos los agentes institucionales sociales

pero también de la oposición y si queremos hacer esa tarea si queremos asumir el reto creo que es importante partir de la realidad del escenario

que ya se están haciendo y siendo también rigurosos dentro de nuestros ámbitos de competencias y no confundir ni tratar de plantear cuestiones que saben que exceden a este parlamento y a este gobierno y centrarnos en las muchas cosas que sí podemos hacer entre todos que por cierto

porque yo me niego a que en debates como estos se trate de deslizar la idea de que hay cosas que se podrían hacer desde euskadi pero que no existe voluntad política para llevarlas a cabo

que no rehúye en ningún debate y con cuestiones concretas les hemos ofrecido ratificarnos en los compromisos adquiridos por este parlamento para impulsar el empleo de calidad les hemos ofrecido instar al conjunto de instituciones agentes sociales y económicos políticos en el ámbito de sus competencias

para reducir la precariedad en el empleo que afecta principalmente a los colectivos de personas desempleadas con mayores dificultades en las que como he dicho se encuentran los jóvenes les hemos ofrecido instar al conjunto de instituciones de la comunidad autónoma continuar desarrollando los instrumentos de los que disponen para el desarrollo coordinado de políticas de empleo

de la integración social y laboral y a favor de la igualdad retributiva y en contra la brecha salarial el desarrollo de una política financiera y fiscal en favor del empleo

les hemos ofrecido instar al gobierno de españa a que en el marco del diálogo social continúe abordando el compromiso de alcanzar un salario mínimo interprofesional que suponga el sesenta por ciento del salario medio como exige la carta social europea

y esto es importante porque se lo decía antes a los socialistas nos parece un error tratar de contraponer las necesidades de unos trabajadores frente a otros

saben que por ejemplo a través de lehen aukera o las ayudas para el ejercicio dos mil veinte para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del programa

la retribución bruta mínima anual exigida ya está por encima de esa cantidad para licenciados diplomados y ciclos formativos de grado superior pero señores de eh bildu vale

euros para la contratación de personas jóvenes oiga y los mayores de treinta y cinco y los de cuarenta y los de cincuenta y los de sesenta

no ve cómo hay que tener una cierta coherencia no ve cómo es contraproducente contraponer

todos tengan garantizado ese salario eso es a través del salario mínimo interprofesional y ese debate es a través de la negociación colectiva y en otro ámbito competencial

como tampoco se puede instaurar ese smi a través de la contratación pública

de álava y de gipuzkoa y lo saben no es una cuestión de voluntad política y lo saben les hemos ofrecido instar al departamento de trabajo a que continúen manteniendo abiertas todas las vías de diálogo y que incorpore las aportaciones

y les hemos ofrecido instar al gobierno vasco a continuar trabajando en la aprobación y puesta en marcha del plan de choque de empleo juvenil con formación dual transición del mundo educativo becas de formación programas específicos de desarrollo del emprendimiento y autoempleo planes locales y comarcales de empleo ofertas de empleo público pues bien a todo esto nos han dicho ustedes que no que ya habían alcanzado una enmienda con podemos y que ya estaba es que no han querido ni hablar con nosotros para intentar llegar a ese acuerdo es que no han querido ni hablar con nosotros

espero sinceramente que en algún momento ustedes decidan coger el guante

pero sepan que mientras tanto el mundo no se para y nosotros seguiremos volcados en dar todas las soluciones que están en nuestras manos a un problema que nos atañe a todos

eta ekonomia suspertzea como decía el programa de gobierno dos mil veinte dos mil veinticuatro es el ejemplo más realista para hacer frente a las nefastas consecuencias

siendo esto así el primer eje de actuación de este programa es el empleo y la reactivación económica adquiriendo como compromiso y como área de actuación el empleo como prioridad por lo tanto como dijo en su día mi compañera itxaso berrojalbiz que hoy no se encuentra aquí pero seguramente me estará escuchando no tener esto claro es no leerse la primera página del programa de gobierno

que serán cruciales para asentar las bases de una recuperación

esto supondrá inversiones para apoyar el mantenimiento del empleo en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores y trabajadoras

para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo

beste askoren artean teniendo en cuenta todo lo expuesto profundicemos y concretemos aún más este programa marco que comentábamos introduce como iniciativa la aprobación y puesta en marcha de un plan de choque de empleo juvenil que acabo de mencionar con el compromiso de facilitar una primera experiencia

transición del mundo educativo al mundo laboral desarrollo del emprendimiento entre otros muchos más programas para reducir la precariedad en el empleo especialmente en el colectivo juvenil todo ello lo incluimos también en nuestra enmienda

y últimamente continuos en todo lo que respecta a llegar a un acuerdo con los grupos que apoyamos al gobierno es más fácil llegar a este atril y hacer un discurso destructivo es que hori oso erraza da hori nik be ahal dut egin

haremos lo que haga falta para mantener todo el empleo posible y recuperar todo el empleo perdido

gracias señora presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios

ser joven en la época actual la juventud se ve limitada dirigida y conformada por un régimen político que quiere marcar con un paso

desde las administraciones se dice constantemente a los jóvenes lo que deben pensar lo que deben sentir lo que deben hacer incluso hasta el idioma en el que deben hablar

a pesar de vivir en la comunidad más rica de españa algunos de los que más difícil lo tienen para salir adelante el desempleo se sitúa por encima del veinte por ciento los sueldos son irrisorios y la temporalidad está a la orden del día lo cierto sin embargo es que nuestra sociedad se enfrenta a dos retos mayúsculos en un futuro no muy lejano por un lado

que lidera la sociedad civil y política en nuestro presente y que debe ser

por otro lado el invierno demográfico pues sin niños sin jóvenes el futuro será la senectud el abordaje de estos asuntos pasa por poner todo nuestro empeño en ayudar a los jóvenes ellos evidentemente son la solución

centremos nuestros recursos en garantizar dos cosas empleo de calidad y emancipación y es que la consejera

dijo el otro día que los jóvenes se emancipan a los treinta años eso es tanto como decir que no se emancipan pero cómo se van a emancipar

de alquiler y cobran básicamente eso cómo se van a emancipar si tienen que dar el veinte por ciento de entrada de un piso y dados los precios del país vasco

se trata de una cuestión de prioridades y creyendo que con una ley de juventud

el problema es estructural y compartido con el resto de españa en mayor o menor grado tenemos

esto no se soluciona nuestra propuesta pasa por mejorar el acceso al mercado de trabajo pasa

a nuestros jóvenes fomentar su empleo con la exoneración de las cargas sociales a empresas y es que sabemos que una vez dentro de las empresas su preparación y dedicación

ustedes son conscientes de que con sus políticas han generado que nuestros jóvenes se vayan a trabajar fuera tanto a otras comunidades de españa como a otros países

un cincuenta y siete coma uno por ciento de nuestros jóvenes está dispuesto a abandonar el país vasco a cambio de un trabajo interesante además son jóvenes preparados y con gran capacitación laboral

a los que dejamos escapar por nuestra ineptitud a la hora de ofrecerles un plan de futuro

me pregunto yo qué es lo vuestro a ver si aquí venimos a contar cuentos es que no lo entiendo muy bien guk badakigu gaur eztabaidara ekarri dugun proposamena

zeniotela un plan potente para recuperar a doscientos jóvenes del desempleo doscientos jóvenes yo cuando me leí el titular pensaba que estábamos hablando de doscientos jóvenes de cada eskualde pero me di cuenta que era de eae

no se le puede llamar un plan potente o ambicioso

nos creemos nuestras propias mentiras y nos creemos que de repente estamos cambiando el mundo y no

y desde este gobierno desde luego el mundo no se ha cambiado atzo aurkeztu genuen guk ere eh bildutik europako funtsei dagozkion gure proposamena eta

también nosotras nos hemos encontrado con un no cada vez que hemos querido

presentado algo sí eso es así eso es así decimos

solamente declaraciones y eso es lo que veíamos en las enmiendas que nos hicisteis

queremos hechos concretos concreciones y cuando hablamos de

no toca porque no queréis porque gobernáis con mayoría absolutísima y me parece maravilloso que gobernéis así se puede hacer

desde la oposición no se hacen propuestas concretas porque sí que las hemos traído posible da

fokua kezkatuta gaudelako y no somos nosotras las únicas que dicen eso y no somos nosotras las únicas que dicen que los programas de empleo juvenil que se plantean desde este gobierno tampoco dan sus frutos lo dicen los periódicos cada domingo cada sábado todos los días y no culpéis a la pandemia de lo que os pasa por capitalistas y colaborar y confrontar nosotras hemos venido a colaborar pero confrontamos con la precariedad konfrontatzen duguna eguneroko bizitza hau da konfrontatzen duguna sistema hau da

sobre cómo son las negociaciones o la voluntad de unos y otros para llegar a acuerdos que desde luego

no es posible porque hay que bajar a lo concreto y

de lo que viene en las iniciativas yo creo que el señor rico hay una parte del argumento que ha utilizado donde ha hecho un poco de trampa cuando usted confronta intereses generacionales a raíz de una iniciativa que va explícitamente

laboral en el mundo juvenil la iniciativa no era nuestra

una enmienda a la totalidad luego hemos transaccionado pero también hemos puesto el foco en la precariedad laboral juvenil

el título de la iniciativa y de eso estábamos hablando y cuando se trae una iniciativa o se propone a cualquier grupo una iniciativa en este caso sobre esto concreto

pretender visualizar que se está contraponiendo los intereses de la juventud con los intereses de otras generaciones que efectivamente también tienen problemas de precariedad en el mercado de trabajo en especial pues colectivos concretos como desempleados de larga duración mayores de cincuenta y cinco etcétera me parece que hay ahí un poco de trampa y creo que no es la intención de nadie contraponer esos

los intereses en este caso son intereses de clase son los mismos

de plan de choque usted sabe que en nuestra enmienda a la totalidad recogíamos instarles a traer ese plan de choque no les proponíamos otro diferente supongo que ustedes estarían de acuerdo sí que incluíamos algunos elementos sobre ese plan de choque

que tiene que ser respecto a objetivos respecto a objetivos cualitativos y cuantitativos

de los millónes que le van a dedicar a ese plan de choque ciento sesenta y dos

es no tanto cuánto sino cómo que es lo que creo de iniciativas buscan porque si estamos hablando de no financiar la precariedad lo importante no es tanto el monto del dinero que se destine a estos planes sino de cómo se ejecutan estos planes y por eso nosotros y por eso yo hablaba antes de lo concreto poníamos medidas concretas que yo sé que algunas no están de acuerdo y de ahí también la imposibilidad de llegar a un acuerdo en este caso al menos con mi grupo porque voluntad había es decir cuando nosotros hablamos de salarios de mil doscientos euros nos por inventarnos una palabra mágica la cifra saben ustedes perfectamente de dónde sale

en los contratos que proceden de financiación pública porque estos contratos se hacen con financiación pública hay que establecer unos mínimos que garanticen

con los problemas que tienen se han hablado aquí de emancipación de acceso a la vivienda etcétera el salario es una parte muy importante y nos parece que todo contrato subvencionado en este caso para la juventud

de mil doscientos euros es importante usted ha hecho señor rico referencia a que para la mayoría de las categorías

aukera ya está por encima de ese salario es cierto pero para las categorías inferiores para determinados niveles de estudios no está por debajo de ese sí para la más baja no está por encima de esos mil doscientos euros debería estar para nosotros debería ser un requisito imprescindible porque la financiación pública de estos programas a cada contrato concreto es muy importante

más de un tercio de ese salario lo está pagando la administración pública en estos programas más de un tercio

unos requisitos mínimos que garanticen la calidad en estos empleos si no podemos influir

cómo vamos a hacer para acabar con la precariedad en el mercado de trabajo más allá

de estos planes usted ha hablado del plan reactívate yo lo he podido leer esta mañana en el periódico no quisiera hacerle

este modelo es el que no debemos defender uno millón de euros doscientos puestos de trabajo salarios de setecientos y pico euros a nosotros nos parece que ese no es el modelo aunque el objetivo sea

laboral las condiciones tienen que ser fijas porque ha existido durante los últimos años

un abuso total además de todo tipo de contratación y de políticas destinadas a la inserción en el mercado laboral de la juventud y se abusa de los contratos de formación de las becas y muchísimas empresas utilizan ese tipo de contratos simplemente para tener trabajadores baratos

y con medidas concretas nosotros por eso poníamos medidas concretas en nuestra enmienda eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

una reflexión pero una reflexión que tampoco dure mucho tiempo y obviamente pasar a la acción ya

jóvenes y los jóvenes vascos es preocupante y sobre todo porque en el escenario actual no ven las oportunidades

actuaciones de los gobiernos yo me voy a dirigir al gobierno vasco porque obviamente estamos instándole continuamente con nuestras iniciativas al gobierno vasco pero sí que creo que corresponde teniendo los datos de la epa yo he dado datos oficiales de la epa y cómo

acaba con un punto y medio superior respecto al resto de comunidades autónomas a la media nacional cuarenta coma cuarenta y cinco por ciento y cuarenta y dos coma sesenta y ocho por ciento somos la cuarta o éramos la cuarta comunidad autónoma con estos datos

y andalucía por lo tanto creo que urge poner

por un plan de choque que tiene que ser la prioridad absoluta de este gobierno en estos momentos y sobre todo por replantearse ciertos programas en relación al fomento del empleo juvenil creo que también tenemos un problema con el talento un problema estructural en euskadi con los jóvenes

más oportunidades fuera no solo en el resto de países de nuestro entorno sino también en otras ciudades de españa y por otra parte lo que no puede ser es que tengamos un servicio vasco de empleo que no sea una referencia para los jóvenes ya lo decía el viceconsejero en la legislatura anterior que el servicio vasco de empleo

para los jóvenes y creo que es algo que no nos podemos permitir y que cuando

yo le pediría a este gobierno que se centre en las competencias que tenemos propias en herramientas específicas que tenemos para ponerlas al servicio de la empleabilidad y en este caso al servicio de la empleabilidad de los jóvenes vascos al mismo tiempo que al resto de las personas desempleadas por ello estamos hablando sin duda del empleo

juvenil yo creo que podíamos haber logrado un acuerdo por lo menos dejando al margen consideraciones partidistas y sobre todo en dos cuestiones

revisar o reforzar los programas actuales existentes creo que hubiera sido un buen ejemplo y creo que

hubieran mirado con satisfacción ese acuerdo esta vez no ha podido ser y espero que en otro momento pues

gracias señora presidenta señora saez de egilaz

sí estoy de acuerdo con usted dice que hemos dicho que no

no nos ha dado la oportunidad cuando se ha ido a debatir esta iniciativa nosotros hemos esperado a que ustedes como grupo proponente se pongan en contacto con nosotros bien pero veníamos de trabajos previos

veníamos de una moción consecuencia de interpelación en la que habíamos hablado usted y yo y en la que incluso bueno yo creo que podía haber

de entendimiento que aprecio que aprecio pero claro resulta que en ese avance en la moción consecuencia de interpelación

aconsejo a todo el mundo que lea ustedes nos decían cláusulas sociales impulsar los instrumentos que tienen en vigor las administraciones públicas

los empleos de calidad nos hablaban la opción de establecer un salario mínimo del sesenta por ciento

y curiosamente cuando acercamos posturas y se recogen en la misma enmienda que yo le he dicho que le hemos ofrecido esa moción

con otra postura los socialistas no cambiamos de opinión cada diez minutos no sé eh bildu pero nosotros con cosas serias

no cambiamos de opinión cada diez minutos y yo creo que este es un ejercicio de funambulismo

vértigo absoluto el hecho de acordar pero es lo que pueden hacer mejor para solucionar problemas y se lo digo lo volverá a intentar lo volverá a intentar pero por favor no diga que le hemos dicho que no eso es mentira nosotros no le hemos dicho que no

usted me ha trasladado que tenía un acuerdo con podemos

para intentar llegar a un acuerdo sobre la base de la moción consecuencia de interpelación

que decía que podía ser interesante y que podríamos entrar porque no es verdad que no llegamos a acuerdos con la oposición yo con podemos tengo acuerdos muy importantes sobre empleo decente los socialistas vascos

con podemos por el empleo decente socialistas y partido nacionalista vasco son ustedes los que nos están diciendo constantemente no y para que haya baile se necesitan a dos personas me decían también

es porque tengo una reflexión hecha que creo que usted comparte y es la de que para dar un empleo de calidad hace falta salarios dignos

y creo que usted lo comparte al menos yolanda díaz lo comparte

que no es de mi partido es del suyo y claro

que a mí me sorprenden algunas cosas que podemos haya entrado me sorprende por ejemplo en un término que no termino de entender sobre todo oyéndole haber dicho algo que yo comparto que es que los convenios se mejoran los mejoran los sindicatos con la negociación colectiva

colectivo propio de la juventud yo no sé yo no sé qué es eso no sé si es que están pidiendo que los gobiernos pasen a sustituir

de verdad si es interesante abordar un convenio para jóvenes como también creo que no sería interesante abordar con convenio solo por ejemplo para mujeres no es que no va así y a mí me sorprende que ustedes hayan entrado pero hay otra cosa que todavía no me sorprende más

hechos me dicen que si no podemos incidir desde la contratación para evitar la precariedad laboral incluyendo por ejemplo este tema de los mil doscientos euros que qué podemos hacer

muy rápido porque si esto es una voluntad política yo me imagino que ustedes la tendrán donde gobiernan

he recogido todos los pliegos de contratos del ayuntamiento de galdakao donde ustedes gobiernan y las condiciones laborales

en ninguno salario mínimo interprofesional o convenio colectivo

y esto yo ya lo había vivido y cuando lo viví en las juntas generales de bizkaia

junto con eh bildu y hemos hecho el mismo ejercicio contratación pública del ayuntamiento de durango toda revisada en los últimos meses gracias al portal de contratación pública de euskadi puede acceder cualquier ciudadano esto es voluntad política dónde está entonces la voluntad política de podemos y de eh bildu incluyendo los mil doscientos euros en la contratación pública es que saben que no es voluntad política es que saben que mediante la contratación pública no se puede imponer el salario mínimo interprofesional de mil doscientos euros amaitzen joan termino señoría presidenta

que podemos hacer aquí se pueden solucionar problemas el problema

sin ninguna vocación de acuerdo gracias eskerrik asko rico jauna

bueno aparte de mítines a veces algunas historias también ya escuchamos algunas para no dormir

es que no hemos dicho que no es que ni siquiera hemos tenido opción de decir sí no o todo lo contrario

eh bilduk gobernatzen duen herrian gobernando con mayoría absolutísima

politikoagoa dela pentsatzen dut ez pues bueno igual nos pasará por capitalistas

aurkeztu eta defendatzeko buenos días señora presidenta gracias consejeros señorías
buenos días a todos bien retomamos

esta ampliación que ustedes han oído hablar de ella de la ampliación de esta magnífica extraordinaria pinacoteca de arte clásico de arte contemporáneo pues ha levantado algún

jurídico en diferentes sectores además de la defensa del patrimonio cultural en bilbao no además de lo que

jurídicos o informes técnicos el proyecto del arquitecto

de una simple reforma en relación con lo que nosotros hemos atendido y hemos visto no independientemente de los pasos

se hayan ido dando en esas decisiones en relación con esa ampliación el ayuntamiento de bilbao y de otras instituciones fundamentalmente el ayuntamiento y sus planes

informes y hay un debate en relación con informes en este momento hay un informe elaborado por

informe externo asumido por el gobierno vasco por

elaborado por la comisión de monumentos de la academia de san fernando

no respeta la ley de patrimonio claro eso enciende luces rojas porque un proyecto elaborado por una comisión técnica de estas características pues que dice que algo incumple una ley pues nos tiene que llamar la atención

una moción que fue consecuencia de la interpelación que tuvimos con el señor consejero hace unos días y hemos dicho en esa moción que

inste al departamento de cultura y política lingüística del gobierno vasco a que en cumplimiento de los artículos tres punto dosf y siete punto tres de la ley seis barra dos mil diecinueve

realice el informe propio preceptivo y vinculante en relación

para el proyecto de ampliación y reforma del museo de bellas artes de bilbao

la ley que aprobamos recientemente en la pasada legislatura pero recientemente en dos mil diecinueve el nueve de mayo de patrimonio cultural vasco en el artículo tres ámbito competencial

al gobierno vasco establece en el punto f realizar el informe preceptivo previo sobre las normas y planes que afecten al patrimonio cultural vasco bueno pues de eso estamos hablando y esa es nuestra moción desde luego nosotros

podemos que establece un plazo temporal de sesenta días

aprobable desde luego por nuestra parte y por qué presentamos esta moción pues bueno debatimos la interpelación

y este consejero dio por bueno los pasos dados en el proceso de concurso de la reforma y ampliación del museo de bellas artes de bilbao

bueno el informe asumido por su departamento y que en ese momento estaba contestado por otros informes además por alegaciones por determinados debates públicos a través de

e incluso por recursos ante los tribunales en esta fase previa de empezar con esa ampliación definitivamente

y por eso mismo queremos seguir en este ámbito de la seguridad jurídica

sobre este tema el señor consejero dio por buenos los pasos dados pero nosotros entendemos que hay dudas en relación con esos pasos dados y queremos solucionarlas

y nosotros entendemos que debemos dar luz sobre si el proyecto agravitas así se llama la propuesta

queremos dar luz sobre si eso como han dicho algunos colectivos

vulnera determinados artículos de la ley de patrimonio cultural vasco eso es lo que nosotros queremos pretender en relación con este tema

además esta moción se agarra a que hemos preguntado

la opinión sobre el informe de la real academia de san fernando y nos ha dicho que no ha opinado que no ha respondido que no valora ese tema

y respondibles desde luego en el debate jurídico que plantea y pensamos que sí que es necesario responder a algunas preguntas que quedan

que se han planteado y no solo las respuestas están en los monosílabos

las preguntas del señor estarrona no hoy las respuestas tienen que ir más allá y tiene que cumplirse realizarse efectivamente ese trabajo que queda pendiente del artículo tres f que he mencionado antes de la ley de patrimonio

una ley importante que aprobamos la pasada legislatura y que establecía una nueva forma de garantizar el buen cumplimiento de la defensa del patrimonio cultural en esta tierra

y nosotros lo que queremos es despejarlas somos parlamentarios presentando esta moción ante esa disconformidad entre el informe sobre la ampliación

del museo de bellas artes de bilbao asumido por el ayuntamiento de bilbao por el gobierno vasco y la seria discrepancia del informe técnico de la real academia de bellas artes de san fernando también la plataforma cívica

relevantes vinculadas a la cultura economía etcétera de bilbao

van más allá de una plataforma que incluso podrá asistir a los tribunales

algunas pretensiones bueno nosotros igual pretendemos un paso previo y saber

lo importante se ha puesto sobre la mesa y es el posible incumplimiento de la ley

de sus artículos y por eso la presentación de una moción sencilla

es un informe al centro vasco de patrimonio en relación con el cumplimiento de la ley un informe sobre una actuación que está previsto se vaya a realizar

y ofrece dos un informe que no se ha hecho por parte del departamento de cultura en concreto por los técnicos del centro de patrimonio cultural de euskadi ya que lo que

un informe externo que no es lo establecido desde nuestro punto de vista y desde el análisis que hacen otros expertos en la ley de patrimonio cultural vasco para estos casos no lleva

este tipo de actuaciones no lleva la firma de responsables técnicos del centro de patrimonio y que entendemos que es muy importante cuando hay una afectación de tal característica al patrimonio cultural

el informe elaborado por la comisión de monumentos de la real academia de san fernando ahí está

experto hablando de una cuestión que afecta al patrimonio al patrimonio cultural el informe

academia de forma categórica se indica que el proyecto agravitas va en contra no

de la ley nueve barra dos mil diecinueve lo dice claramente en su informe el informe dice que a su juicio se vulneran entre otros los siguientes artículos que

no solo contradicen sino que precisan y desarrollan los contenidos del artículo treinta y nueve de la ley de patrimonio histórico español es decir

habla de la vulneración del artículo treinta y cuatro de la ley de patrimonio cultural vasco en relación con los criterios generales de intervención sobre bienes culturales

en el cuatro que se establece como principio básico la actuación la intervención mínima indispensable

cuestión que discute en relación con el proyecto y por eso piensa que se ha incumplido ese artículo el artículo treinta y cuatro punto cinco en relación con las intervenciones respetarán

y proporcionarán información sobre la evolución del mismo también entiende que se vulnera

respetar la armonía del conjunto otra de las cuestiones con las que discrepa

en relación con el artículo cuarenta y nueve en torno de los bienes culturales inmateriales te dice que el entorno perdón inmuebles no inmateriales inmuebles

constituido por el espacio y por los elementos en él comprendidos se hallen o no próximos cuya modificación debe afectar a los valores culturales del bien y a su puesta en valor

con el artículo cincuenta en relación con la prohibición de instalación de elementos que originen

la defensa del patrimonio cultural o ambiental

visual o acústica sobre los bienes culturales y dice que ese artículo uno que entiende que se vulnera que a estos efectos de esta ley se entiende

sobre un bien cultural protegido impidiendo dificultando o distorsionando su contemplación y degradando sus valores contextuales esto lo dice la real academia también expertos

lo han puesto de manifiesto este enfrentamiento entre este informe de la real academia de san fernando que es la institución artística

y mayor vigencia cultural en españa y órgano oficial además que se ha pronunciado

asumido por el director de cultura del gobierno vasco realizado de una manera externa al centro vasco de patrimonio

que nosotros tratamos de hacer en la moción que antes les he presentado

a una decisión polémica y tenemos los instrumentos

que nosotros mismos muchos de los que algunos de los que estamos aquí hemos debatido y sobre la que hemos y que finalmente este parlamento aprobó y tenemos los instrumentos necesarios vuelvo a decir

que va a ser luz urbanística que va a ser luz cultural que va a ser luz ciudadana

proceso que se va a judicializar

de actuación nosotros vemos que puede haber en un informe técnico con todos estos antecedentes de los que hemos hablado de los que

dispone la opinión pública pues una posible solución a un conflicto arquitectónico en relación con el museo de bellas artes de bilbao por eso entendemos que la confección por parte de los técnicos

los especialistas podría ser una buena fórmula de ver cómo se cumple de verdad

se cumple la ley sí se cumple qué es los artículos referidos dónde está

si el museo necesita una ampliación desde luego esta deberá hacerse bien hay que hacerse bien lo tiene que hacer bien jurídicamente

al plan general al urbanismo en bilbao y a otras cuestiones de las que ya hemos hablado es

de esas características hemos dicho que el museo de bellas artes es una joya cultural

por la importancia de sus colecciones y la importancia de la historia de las mismas y de su desarrollo en estos últimos decenios

sobre el proyecto actual el que está aprobado en principio o que se cumpla la ley si no se cumple

todas esas cuestiones son al margen pero que se cumpla la ley porque si no

esa es nuestra posición la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno va en el sentido completamente

de la opinión del consejero pero nosotros vemos serias dudas ahí está el debate muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el tenebrismo es una corriente histórica de la historia del arte donde de forma muy forzada

que nos ha presentado agravitas vemos más sombras que luces en su realización

no cuestiona ni el valor estético ni las necesidades de ampliación del museo lo que aquí se está poniendo en cuestión es la legalidad de cómo se ha realizado la adjudicación

el proyecto arquitectónico cumple los requisitos administrativos para ser realizado lo primero que nos llama la atención en este concurso

es la forma en la que se realizó la adjudicación del proyecto al estudio de norman foster y uriarte

en el patronato del museo estaba una de las personas

y no se puede ser juez y parte al mismo tiempo no hay igualdad de trato en este jurado seguidamente el proyecto ganador

y se expuso al público durante el mes de agosto y el mes de septiembre lo que viene a ser

a estas dudas iniciales hay que añadir el informe elaborado por la comisión de monumentos y patrimonios de la real academia de san fernando que alertaba sobre las irregularidades del proyecto y nos advertían que

de la nueva ley de patrimonio cultural vasco vulneraciones que al gobierno vasco parece ser que no le importan estamos hablando de un edificio que ha sido declarado monumento histórico artístico en mil novecientos sesenta y dos después en mil novecientos ochenta y cinco bien de interés cultural

fue nombrado bien cultural calificado y con la ley seis barra dos mil diecinueve

más novedosa ha sido considerado bien de protección especial

al mismo tiempo el ayuntamiento de bilbao en su plan de ordenación urbana ha catalogado al edificio

afectándole también la anterior normativa que es la máxima protección que puede dar el ayuntamiento a una obra

pues a pesar de todo lo mencionado el proyecto ganador a grávita

distorsionando completamente la imagen del edificio es más que evidente que el concepto y el lema de concurso ampliación y reforma del museo

este proyecto no es una ampliación en el sentido arquitectónico determinado la propuesta de ampliación es

superficie útil del actual museo es decir es un nuevo edificio

las alineaciones de la fachada y supera en todos los parámetros de volumen longitud y altura la del edificio actual por lo tanto

que se trata de una intervención mínima como señala el artículo treinta y cuatro punto cuatro de la ley de patrimonio en el interior

lo cual también va contra el artículo treinta y ocho de la presente ley que dice que solo se podrá actuar sobre cerramientos particiones y carpinterías y aquí es donde llegamos

a la iniciativa que ha presentado el partido popular que es en el artículo cuarenta y siete

dicho informe tendrá carácter preceptivo será vinculante

y será vinculante en las determinaciones correspondientes a estos bienes y deberá ser emitido en el plazo de dos meses y yo me pregunto tenemos del gobierno vasco estos informes esta competencia es irrenunciable la legislación obliga a la emisión de estos dos informes el urbanístico y el ambiental ambos imprescindibles para tramitar la aprobación del plan especial que se necesita para el citado proyecto en cuanto al exterior del patrimonio

bastantes cambios según el artículo cuarenta y nueve

y según el artículo cincuenta tenemos contaminación visual y esto se produce así porque el arquitecto ha proyectado una fachada de quince metros son

que sale sobre el parque esto

que establecía que aquí solo se podía hacer una inversión urbanística

en el exterior también entre los diversos elementos ornamentales y escultóricos que rodean al perímetro del museo de bellas artes está el monumento

mil novecientos treinta y tres y que fue hecha por concurso público todo lo contrario que esta intervención que fue por

y entre ellos se eligió a uno esta escultura está integrada en el proyecto actual está integrada dentro del propio museo y a nosotros esto nos parece una mutilación del espacio público

que por mucho cristal que pongamos sigue siendo una privatización del espacio público y por otro lado el atrevimiento es tal que se desvirtúa totalmente el carácter fuente de la obra

que lleva aparejada es como si a la escultura de gernika le quitamos los trozos del árbol de gernika

que se parezca y exteriormente parecerá la misma pero toda la simbología ha sido eliminada y después de este recorrido y después de haber visto todas las sombras que nos suscita este proyecto volvemos a preguntar

los miembros que sustentan al gobierno si tenemos el informe favorable del departamento del gobierno vasco competente en materia de patrimonio cultural que tendrá carácter preceptivo y vinculante que debe ser redactado por los técnicos

del centro de patrimonio cultural porque para qué nos sirve dotarnos de leyes y establecer categorías si las personas que tenemos que defender estas leyes

vemos una clara voluntad política turística y comercial revestida de una intención cultural es el uso otra vez una vez más de la cultura

andrea sailburu egun on guztioi bueno el debate de hoy considero que en absoluto pretende cuestionar la importancia del museo de bellas artes

como pieza clave en la difusión de nuestra cultura y nuestra identidad en todo el mundo yo creo que esto es una cuestión en la que estamos de acuerdo todos todos los grupos que conformamos esta cámara por lo tanto sirvan estas primeras palabras para poner en valor

de bilbao en la ya centenaria historia y si se me permite quisiera también aprovechar para realizar una especial mención a la osadía y acierto de la actual dirección con una atrevida apuesta por situar el museo en la vanguardia museística internacional

quisiera dividir mi intervención en dos bloques

uno más centrado en el procedimiento administrativo y otro en el que pretenderé aunque brevemente entrar en el fondo de la cuestión porque señor barrio este parlamentario

de leyes y artículos hay algo de fondo y yo quisiera reflexionar aunque fuera brevemente sobre ello entrando en materia comencemos por el principio siguiendo lo indicado por la ley de patrimonio cultural vasco el gobierno vasco presenta dos informes para la tramitación del plan especial del museo de bellas artes de bilbao el primero por cierto al que nadie hace referencia firmado por la catedrática de historia del arte de la universidad de salamanca profesora maite paliza el segundo

de la cátedra unesco de paisajes culturales y patrimonio de la universidad del país vasco euskal herriko unibertsitatea y que está firmado por agustín azkarate

y director del grupo de investigación en patrimonio construido de dicha universidad leandro cámara arquitecto y director técnico de la fundación catedral santa maría

investigador del grupo de investigación en patrimonio construido así como investigador de la citada cátedra unesco así que los informes han sido presentados en tiempo y forma como marca la ley está fuera de toda duda además que ambos informes han sido elaborados de reconocida solvencia científica y en el caso del segundo informe del que tanto se habla por expertos cuyo currículum es de sobra conocido más allá del ámbito académico

porque aquí en vitoria gasteiz sus nombres siempre estarán vinculados al gran éxito en la restauración de la catedral de santa maría la tramitación

seguirá su camino hasta llegar al pleno del ayuntamiento de veintiséis de noviembre del pasado año

siguiendo la línea cronológica el veinticinco de enero de dos mil veintiuno la academia de bellas artes de san fernando presenta un informe

cuestionando el proyecto es decir dos meses después

insisto cuando la decisión ya estaba tomada y es a partir de este momento cuando el partido impulsa diferentes iniciativas tanto en el ayuntamiento de bilbao como hoy aquí en este parlamento insisto aun a riesgo de parecer pelma cuando la decisión está legítimamente tomada y aprobada por los votos de la mayoría del pleno municipal de bilbao y terminando con esta cuestión porque me parece que no requiere tampoco de mucho más tiempo

para poder posicionarse con criterios técnicos más que suficientes no hace falta ningún informe pero ahora sí que quisiera pasar al fondo de la cuestión un tema que por lo menos en lo que va de debate yo aquí no he escuchado

por un museo de qué hablamos cuando hablamos de un museo y como la mejor forma de definir nuestras palabras es acudir al diccionario me he permitido

la licencia de recurrir al diccionario de la real academia de la lengua

y haciendo un mix de ambos definiciones he intentado hacer la definición más completa posible de qué entendemos por museo

convenientemente colocados para que sean examinados exhibidos y estudiados con el fin de su conservación estudio y exposición sirviendo también de atracción del interés público

es decir siguiendo los criterios de otra de nuestras reales academias es imposible separar contenido y continente

quizá esta sea la razón por la que se ha arrinconado en todo este debate el citado

es clara y meridiana así pues el vínculo indivisible entre museo y colección no es el capricho de ningún arqueólogo

una unidad básica el museo de bellas artes que podemos ver hoy

en el que se pueden apreciar las diferentes formas en las que los poderes públicos han entendido la función del museo y su interacción tanto con la ciudad como con la ciudadanía en otras palabras lo que tenemos ante nosotros es la materialización de las diferentes formas en las que bilbao y sus habitantes han entendido y vivido su museo una evolución histórica que paradójicamente ha terminado arrinconando al edificio original relegándolo a un papel secundario

asumir la indivisibilidad del binomio contenido y continente

el edificio original está ahí impoluto pero la evolución del museo la evolución del proyecto museístico a lo largo del siglo veinte lo que ha hecho ha sido irlo arrinconando irlo aportando y condenándolo

función meramente secundaria por eso es tan importante concebir el museo como la interacción entre contenido y continente no es un edificio es un edificio que contiene

contiene diferentes cuestiones para su exposición el proyecto actual por tanto ha de ser comprendido a mi modo de ver como una nueva intervención encaminada a adaptar el museo

como el medio ambiente la inclusión social o la sostenibilidad económica es por tanto adaptar nuestro museo de bellas artes a las nuevas formas de entender las funciones que un museo ha de tener para una ciudad del siglo veintiuno

que ha de ser aislado y protegido del paso del tiempo el museo su colección su proyecto museístico

que ha de ir evolucionando según lo hace nuestra forma de enfrentarnos interactuar con la cultura

pero permitamos que la nuestra conviva con el pasado desarrollando su visión particular de lo que entiende y quiere que sea el museo de su época me imagino

mientras se debate hay que tomar decisiones hace ya treinta años que vivimos un debate parecido con la creación del guggenheim

y realmente interesante pero más allá de las lógicas diferencias

explícito al proyecto partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi

hoy parece ser que una vez más volveremos a ser los mismos

y demos el empujón que el museo de bellas artes y la ciudad de bilbao necesitan nada más muchas gracias eskerrik asko

kultura gizartea aldatzeko faktore gisa hartzen duen ikuspegiari esker la cultura es una gran palanca de cambio y el museo de bellas artes

fruto en más del setenta por ciento de donaciones y legados que regularmente sigue recibiendo es una de las principales piezas que tiene nuestro país para accionar esa palanca el museo de bellas artes es un modelo de cómo

la comunidad artística local y las instituciones públicas configuran y hacen crecer el museo y sus colecciones y ahora de nuevo necesita adaptar sus instalaciones

decía usted señor barrio en su interpelación y abro comillas parece apuntar que será una intervención más allá de una simple reforma efectivamente

única para elevar a una nueva dimensión que trascienda su realidad actual este espacio museístico un espacio que adquirirá una nueva personalidad artística arquitectónica y medioambiental un lugar para artistas y creadores y para la ciudadanía museoa handitzeko eta eraberritzeko proiektuaz ari gara gaur

eta hau zergatik porque respeta lo existente mantiene todas las construcciones anteriores e incluso permite ver en una única imagen a golpe de vista toda la historia del museo con todas sus transformaciones porque recupera lo perdido

la entrada principal la original de nuevo será por la plaza euskadi porque se mimetiza con el entorno inmediato respetando el paisaje vegetal y visual y porque proyecta el museo hacia el futuro con nuevos espacios para exponer los fondos para investigar para restaurar y para educar

handiagoak edo txikiagoak egin ditu desde entonces este ha sido el período más largo sin obras hasta que en dos mil dieciocho el patronato del museo aprueba el plan estratégico dos mil diecinueve dos mil veintidós y el máster plan de la ampliación

las obras de los y las artistas y creadores actuales exigen por sus dimensiones y volumetría otros espacios adaptados a su envergadura necesidad de mejorar una circulación interior que se había vuelto caótica con tantas obras reformas y añadidos necesidad

hoy nadie entiende los museos en ninguna parte del mundo sin esta infraestructura se han vuelto imprescindibles necesidad de conectar las dos entradas y de acomodarse a la nueva plaza euskadi que servirá de ampliación al parque de doña casilda de iturrizar y hará

alejando el bullicio de coches de la puerta de entrada del museo que pasará de nuevo a ser la puerta principal

como tecnológica en su imagen humanística en su enfoque ecológica en su sostenibilidad y una calidad arquitectónica sensibilidad urbana

integra todas las obras y reformas sucesivas que se han realizado en el edificio original

y de nuevo como fue en cada una de las ocasiones del pasado recurre a la arquitectura más vanguardista para dar solución a todos los retos que se le plantean

las propuestas eran también la vanguardia del momento resuelve la necesidad de espacio integrando el museo en el nuevo espacio que se ha creado a su alrededor

mimetiza en el entorno una nueva visión del museo y una nueva armonía entre la historia y la modernidad que contribuye a la grandeza de su imagen

lógica que respeta como las anteriores reformas la época y el museo el universo simbólico y la creatividad humanas son infinitas y es imposible contenerlas en un espacio único cerrado e inmutable lo mismo que la creatividad humana evoluciona no tiene límite los espacios para acogerlos también han de experimentar esos cambios y adaptarse pura lógica kasu honetan

aunque realice cambios y que realiza cambios respetando el patrimonio ondarea aldatu berritu eguneratu eta errespeta daitekeelako

reproducir los debates que en su día vivimos con el guggenheim no son fáciles de olvidar pero de nuevo agradecemos a las instituciones

y procesos rigurosos y nos hemos ilusionado y mucho el museo de bellas artes tiene ciento doce años es una extraordinaria pinacoteca

y tiene que resolver los retos que se le plantean patronatuak eta erakundeek berrikuntzaren eta nazioarteko proiekzioaren alde

señora presidenta y bueno agradezco al señor angulo sus aportaciones a la cuestión también en relación

nos ha dado tiempo en la primera parte a hablar de cosas de contenido donde usted sí que ha entrado en relación con aspectos importantes y bueno y agradezco también su enmienda que nosotros apoyamos

con el valor del museo con las fórmulas que tiene que haber las vanguardias

desde luego yo no he descalificado el informe de azkarate cámara azpeitia yo lo tengo como algo que está ahí en el debate

por el gobierno pues bueno su valor tendrá y su valor tiene yo no soy experto así que y ahí está

y este informe ha sido no ha sido de oficio de la academia sino que ha sido a iniciativa ciudadana o sea que en ese sentido es importante o sea que eso de los tiempos

alguien se ha preocupado por alguna decisión que le ha preocupado y sobre la que ha pedido luz pero yo le pregunto vuelvo a decir completamente de acuerdo con las reflexiones que ha hecho sobre la museística y sobre

ese debate está ahí y se pone de manifiesto pero a usted le parece relevante el informe de la academia de san fernando

le parece relevante luego me lo contesta por favor y a la señora zuluaga yo como usted yo conozco la colección pero buena parte

la he admirado durante muchos años he tenido la oportunidad de ir allí

excelente director que tiene esa pinacoteca y estar comisión de cultura y estar por mi cuenta y disfrutar de esa

seguir preservando desde luego para el futuro

en algún caso en relación con lo que pasa o con lo que tiene que haber en las reformas lo que ha dicho usted son

o una interpretación artística o de movilidad yo lo que le pido es una y lo que le pido a la cámara es una certeza legal

claro que una actuación de estas características

resuelve problemas de espacio por supuesto que resuelve problemas de espacio eso está clarísimo claro mire usted los dieciséis metros que eleva

o de acceso o de comunicación interna bien no es la cuestión esa no es la cuestión y a usted le pregunto lo mismo a usted le parece

el informe de la academia de bellas artes de san fernando que dice cosas muy serias en relación con lo que nosotros tenemos obligación de preservar en relación con el cumplimiento de la ley de patrimonio cultural del patrimonio cultural vasco

esas son las cuestiones y las dudas que se deben resolver porque mire para atraer a los turistas no hay que incumplir la ley

puede ser muy llamativo algo que igual lo tiene que ser y lo puede ser pero primero vamos a despejar esas dudas esas dudas

artes que se lo traen los bilbaínos en este caso muchos y técnicos y un informe de un órgano experto ese es el elemento fundamental y usted ha mencionado al jurado también es que las cosas hay que hacerlas bien

está un miembro de la fundación foster pues no está bien el asunto

a foster tiene un miembro de la fundación foster ya sé que luego se aprobó por unanimidad pero no está bien todos tenemos que cumplir cosas muy estrictas

la mesa de este parlamento tiene que aprobar muchos concursos sabe que las incompatibilidades que hay sabe las cuestiones que hay que cumplir pues nos llama la atención en cualquier caso

qué les parece el informe de la real academia de san fernando en relación con las

con el incumplimiento de esos artículos de la ley vasca de patrimonio muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos ezker anitza

a raíz de la intervención del señor alonso en la cual ha hecho la definición de

me he acordado yo de que durante un llevan un par de años discutiendo en el icom una nueva definición de museo

voy a leerla porque no me la sé esta dice entre otras cosas los museos no tienen ánimo de lucro son participativos

no hay ni participación ni transparencia trabajan en colaboración activa con y para las diversas comunidades aquí tampoco tenemos colaboración activa

que no le dejan participar y luego sigue confeccionan preservan investigan interpretan exponen amplían

dignificar a la humanidad y la justicia social la igualdad mundial y el bienestar planetario

de cómo se ha ido haciendo y desarrollando este proyecto este proyecto no se ha hecho con la transparencia necesaria no se ha hecho de forma abierta y clara para la ciudadanía necesita un informe

de patrimonio para poder seguir para adelante se ha usado un informe que por muy prestigiosos que sean azkarate que fue

arqueología tres la dimos todos y

y anterior a empezar el proyecto y en este caso no tenemos esos informes no tenemos los informes que tiene que hacer

el departamento de cultura para cuándo van a estar muchas gracias eskerrik asko angulo jauna

incluso me atrevería a decir que maestro el

sí efectivamente toda la facultad pasó por él y yo vamos no quiero entrar en esa reflexión porque también sería muy interesante y viene también al caso

señor barrio le respondo pero déjeme que aterrizó tranquilo que aterrizo

cualquiera que se haya acercado a esa evolución de cómo pinta un pintor que muchas veces parece que lo hace de golpe y luego descubres pues que efectivamente ha tenido sus dudas

es verdad que la gran diferencia en este caso es que un cuadro una vez terminado se terminó y un museo está constantemente abierto es siempre vivo porque es algo que interactúa con la ciudadanía

igual que existe la reflectología para la pintura para los edificios para comprender porque los edificios están vivos y están

existe la arqueología de la arquitectura por cierto una de las mayores figuras de referencia internacional en esta materia es agustín azkarate o sea esa reflectología esa capacidad de ver cómo evolucionan los edificios y sus usos a lo largo de la historia eso también existe una disciplina

es a quien se le encargó el trabajo porque efectivamente el museo no es el mismo el que se creó allá en la primera mitad del siglo veinte puede ser el mismo el edificio

porque yo creo que esa es y es mi impresión y es mi opinión la de este parlamentario

la diferencia que tenemos el informe de la real academia y yo personalmente

como la unidad a proteger pero yo personalmente considero considero

no podemos simplemente fijarnos en el edificio porque desde mediados del siglo veinte

ese proyecto museístico ese museo no ese edificio ha vivido una constante transformación se ha ido modificando desde la academicismo propio de la primera mitad del siglo veinte

nos dura casi hasta los años setenta ha ido evolucionando se ha ido adaptando y esa es la evolución que ha de seguir realizando

sino que es un proyecto que está vivo porque interactúa constantemente con la ciudad con su paisaje y con la ciudadanía esa es

me parece que el informe de la academia peca desde la humildad

historiador peca de quererse centrar demasiado en el edificio obviando que el edificio en sí no es más que una parte de un binomio contenido continente si usted vuelve a leer si usted vuelve a leer el informe de la academia

y lo ve como un museo como algo vivo como un proyecto museístico que es más complejo que un edificio verá que en realidad esos artículos se cumplen se cumplen no se cumplen cuando simplemente nos obsesionamos y eso lo he dicho también en mi anterior intervención en querer fosilizar un edificio dejarlo bloqueado helado en el tiempo y protegerlo como si esto no fuera con él claro eso lo puede hacer con un edificio lo puede hacer con un cuadro

porque un museo está condenado a la interactuación constante con ciudad paisaje ciudadanía etcétera etcétera entonces yo

el debate de los informes el gobierno un informe sí un informe realizado por un equipo conocido y reconocido y que ha intervenido en otros proyectos e infraestructuras culturales de nuestro país a quienes al igual que otros informes de este mismo proyecto se les ha solicitado análisis

se ha externalizado sí no es la primera vez ni será la última que el gobierno y cualquier otra institución pública lo haga algo absolutamente regular y legal

nosotros como país y cualquier institución nos dotamos de leyes de reglamentos de procesos y protocolos rigurosos para cualquier actividad incluida desde cómo tenemos que establecer y desarrollar aquí una moción o una interpelación hasta cuando hacemos una autopista y en este proceso de la ampliación del museo de bellas artes pues exactamente igual y el informe de san fernando absolutamente

pues no tengo muy claro yo dónde encaja en este esquema de protocolos y procesos para llevar un plan como este adelante los del gobierno

dónde encajaban podemos discutir hasta el infinito sobre todo lo que rodea al proyecto

pero lo cierto es que las instituciones fundadoras y el patronato del museo como se hizo en los ochenta apuestan por la cultura como motor transformador de la economía del urbanismo y el medio ambiente y ahora el museo de bellas artes está otra vez en esa línea todos sabemos del efecto tractor en lo cultural económico turístico

que supone un museo para un país euskadi y el museo guggenheim son un ejemplo emblemático motivo de análisis e imitación

barrio jauna y abro comillas todos queremos que tenga el mejor de los futuros posibles es un proyecto cultural importante

nos dijo y hoy otra vez que se han reunido con el director del museo les ha explicado los pasos en relación a la ampliación y el porqué de esa ampliación izan ere

gaude el departamento de cultura y el resto de instituciones fundadoras y el patronato del museo de bellas artes han participado en la reflexión y en la toma de decisiones desde dos mil dieciocho en el que se aprueba el plan estratégico del museo

por parte del pleno del ayuntamiento de bilbao el pasado mes de noviembre está aprobado aprobación fundada en los necesarios informes

reconocidos y cualificados el plan estratégico plantea la modernización y expansión de su capacidad de actuación en bilbao y euskadi

necesita ampliar espacios de exposición proponer programas de exposiciones y actividades y una proyección internacional los arquitectos norman foster y luis mari uriarte y su proyecto agravitas de reforma y ampliación preservan

patrimonial del edificio y enriquecen el conjunto arquitectónico

bete egiten du impulsemos este proyecto garanticemos su desarrollo que ahora más que nunca servirá para reactivar nuestra economía y también revitalizará

necesitamos ilusión y proyectos innovadores que proyectarán internacionalmente
los valores contemporáneos de nuestra sociedad y su modo de hacer eskerrik asko

es lo habitual no quiere decir que sea lo normal zergatik ez dute jaurlaritzako teknikariek egin txosten hori zergatik

moderna soberana txinoak

no es tan raro que en la sociedad entera en todos los ámbitos estemos hablando con tal propiedad de las vacunas como nunca lo hubiéramos hecho si tenemos en cuenta que las vacunas son precisamente la expresión material en la que se condensan

y las esperanzas de toda no solo una sociedad como la vasca sino casi de toda una civilización horregatik horregatik

tan partida tan dividida casi para todo de repente parecía que se ponía de acuerdo armonizar algunas actuaciones entorno a la vacuna y desde luego también en lograr acuerdos de compra anticipada para asegurar un buen precio

en los países de la unión europea sin embargo esta alegría

en los poderes políticos en los poderes públicos de que parecía que por fin asumían que había que poner los cuidados en el centro

interdependencia y nuestra ecodependencia esta alegría que parecía traernos un nuevo tiempo político se tornó en frustración se tornó en frustración cuando vimos que las vacunas son caras

precisamente donde menos dinero existe en los países en los que menos dinero tienen resulta que van y son más caras

del precio en algunos estados europeos y además no solo que sean caras sino que es que además son insuficientes no llegan en cantidad suficiente y ya también si nos fijamos en la desigualdad

más pobres precisamente en los que las dosis que llegan se cuentan por decenas en contraposición a las dosis que llegan a algunos países europeos que se cuentan por millónes es decir carestía insuficiencia desigualdad pero además insuficiencia también en contra de los contratos que había firmado la unión europea con muchos de estos laboratorios farmacéuticos que nos aseguraban el suministro de dosis y además la sospecha

con que las vacunas acordadas y concertadas con los países europeos

a otros países porque estaban pagando más así que con todas estas sospechas y esta realidad se quiso conocer el contenido de los contratos de la unión europea con las farmacéuticas con los laboratorios y nos encontramos con una opacidad absoluta sabemos que el primer parlamentario europeo que accedió a ver estos contratos dispuso de menos de una hora

extrema y además pudo consultar los contratos que estaban tapados es decir estaban ocultos muchísimos de los datos que eran necesarios para saber

con la falta de suministro de las vacunas con ese insuficiente suministro y con esa desigualdad

distribución de las vacunas así que carestía

desigualdad y además opacidad por qué por qué pasa todo esto cuando teníamos la alegría de que por fin

a este pueblo que estaba sufriendo tanto a esta humanidad que estaba sufriendo tanto cuando por fin teníamos

escuchando a la ciudadanía y favoreciendo los intereses generales por qué nos pasa

un poquito y no hace falta escarbar mucho porque razones puede haber múltiples pero desde luego hay una cuestión fundamental la dicotomía perversa que existe entre que la mayor parte de la inversión económica para el desarrollo de las vacunas haya sido con dinero público y sin embargo digamos la propiedad de la vacuna es decir

y el hecho de decidir cuántas vacunas se fabrican a qué precio y dónde se distribuyen resulta que es cien por ciento decisión

de los laboratorios farmacéuticos que son los dueños de esas vacunas es más en este privilegio

resulta que una de las cosas que sí se pudo saber al estudiar esos contratos es que además los riesgos que pudieran causar estas vacunas no las asumían las farmacéuticas sino los estados por lo tanto tenemos

de vida a la existencia de unos laboratorios farmacéuticos ávidos de ganancias económicas

en la circunstancia que sea aunque sea una circunstancia de pandemia mundial terrible y unos poderes públicos unos poderes políticos que son incapaces no pueden

controlar que eso no sea así si queremos solucionar esto la solución pasa lógicamente por

por replantearnos este modelo de colaboración público privada que se ha generalizado en tantísimos ámbitos y desde luego también en el ámbito sanitario

nos advertían muchos organismos internacionales últimamente también incluso naciones unidas que la privatización

a la covid y desde luego desde luego

de este poder casi absoluto a las farmacéuticas nos ha dejado sin las vacunas necesarias aquí y no digamos ya en otros lugares del planeta que lo necesitan tanto como nosotras porque esta pandemia

y la respuesta que debamos darle tiene que ser también

e igual así que la solución pasa por repensar este modelo y desde luego cuando hablamos de las vacunas por liberalizar las patentes

liberalizar las patentes e invertir también dinero público para que los estados podamos contar

públicas esa es la solución necesaria para hacer frente a este mal que estoy comentando desde luego

en los contratos que se llevan a cabo en esta colaboración público privada en el ámbito sanitario de las vacunas y desde luego asegurar que el alcance

que se crean sea universal y si nos fijamos en nuestro pequeño país

también en euskadi tendremos que aumentar la inversión pública en materia sanitaria en materia también de investigación y de producción de vacunas también podríamos ayudar

a través de la agencia vasca de cooperación y el departamento de salud y desde luego también podríamos contribuir

de euskadi en las instituciones en los órganos internacionales

entre tanto hoy y quiero agradecer también en este sentido el esfuerzo que han hecho por acercarse a estos objetivos al partido socialista y el partido nacionalista vasco hoy hemos podido

acuerdo transaccional que si no alcanza al objetivo que planteaba sí por lo menos que marca un camino y me gustaría

a este acuerdo al que hemos llegado que consiste desde luego además de reconocer la importancia de los avances científicos sí que

se insta a través en este acuerdo se insta al gobierno vasco y al conjunto de las instituciones a avanzar en los esfuerzos es decir no a conformarnos sino a avanzar en los esfuerzos

que la inversión pública tiene un retorno económico y social en lo público también se insta a la comisión europea a actuar con transparencia e informar sobre los contratos con los laboratorios

en este acuerdo también se recoge que el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al gobierno de españa también y a la unión europea a considerar las vacunas como un bien universal de acceso

para que ello sea materialmente posible y efectivo en este acuerdo también se recoge que el parlamento vasco insta al gobierno vasco al gobierno de españa y a la unión europea a la más estrecha colaboración

con este fondo como acelerador bueno sí al fondo covax también se recoge en esta propuesta transaccional

de licencias obligatorias a los estados miembros en previsión de posibles escenarios pandémicos

y disposiciones sean posibles para lograr precios justos así como para completo a los datos fruto de las investigaciones realizadas con aportaciones públicas y también se insta al gobierno de españa a implementar

de acceso universal finalmente también se insta al gobierno vasco al gobierno de españa y a la comisión europea a que se incremente

de políticas de cooperación para fortalecer los sistemas sanitarios en los países en vías de desarrollo creo que el acuerdo al que hemos llegado es un buen acuerdo no es

es un buen comienzo con ese horizonte enfrente así que muchas gracias eskerrik asko gorrotxategi

muchas gracias presidenta consejero consejera

señorías buenos días de nuevo no han repartido la enmienda de transacción

pues estáis firmando ahora bueno la ha leído la señora gorrotxategi así que algo me he quedado con lo sustancial o sea que yo creo que podrá ser

que el objetivo de la pnl es un buen objetivo lógicamente es un debate que está ahí que no

en muchos ámbitos y en ámbitos muy importantes donde van a tener que tomar

desde nuestro punto de vista vista la iniciativa original que es la que de momento puedo hablar aunque bien conozco ya de oídas la transacción

imposibles de resolver por este parlamento por su gobierno vasco ni siquiera con voluntarismo es decir con el voluntarismo de instar

no había posibilidad de que obtuviese el apoyo de este grupo ese texto inicial ahora parece que efectivamente se han concretado las cuestiones que es posible que

gobierno de españa pues también puedan hacer nosotros tenemos la vista puesta en este tema por supuesto

necesidad esencial de ser todos vacunados nos hace pensar

en los que no lo pueden hacer por las condiciones económicas

tenemos que ser agentes y que la sociedad europa y el mundo tiene que ser agente

menos desarrollados o con menos posibilidades más empobrecidos esa vacuna tenga acceso

el tema de la liberalización de las patentes pero también habrá otras fórmulas en ese sentido yo espero a lo que regule en este caso el elemento de referencia

la unión europea hay que resolver muchas cuestiones en relación con la posibilidad del acceso a las vacunas en todo el mundo

porque bien de momento la fabricación de las vacunas es escasa están llegando

hay dificultades pues esos son los elementos que hoy hay que resolver esa fabricación y el hecho de cómo acceder y cómo identificar los problemas y cómo ser solidarios por eso ese debate está abierto a iniciativas sobre la mesa sobre esta cuestión

organización mundial de la salud vemos también la disposición de determinados gobiernos bueno o sea que es un elemento que hay que conjugar pero

lo que tenemos que apostar es por la vía de la solidaridad de la cooperación y entonces nosotros ante la imposibilidad de aprobar

esa proposición no de ley tal y como estaba redactada habíamos presentado una enmienda pero se podía decir que era una enmienda general pero la posibilidad de que el parlamento vasco inste al gobierno vasco al gobierno de españa a la más estrecha colaboración con covax que es el acelerador del acceso a las herramientas contra la covid diecinueve que como saben ustedes

hace prácticamente un año formado por gobiernos organizaciones internacionales como la oms o el banco mundial y otras instituciones público privadas que tienen mucho que decir en el proceso de fabricación de las vacunas

y en ese sentido para promover a partir de ahí ese acceso a las vacunas contra la covid diecinueve

pretendíamos desde luego con nuestra iniciativa también quizá voluntarista

para terminar estos días a raíz de esta iniciativa

de las posibilidades de llevar a cabo cuestiones como la liberalización de las patentes ahí están

lo que tiene que haber es alternativas algún artículo de diarios económicos en relación con la salud hablaba de liberar la paciente de la vacuna idear realizable u ocurrencia está bien claro que no que no es así como hay que plantearlo hay que plantearlo

ser conscientes y capaces es de que la vacuna llegue a todo el mundo

y yo creo que la conciencia está ahí la conciencia de la unión europea de sus estados miembros

que eso sea posible y bueno pues yo creo que aprobaré la enmienda el texto transaccional

en todas partes solo hay una manera de convertir las palabras en realidad apoyar la extensión del acuerdo sobre el adpic

difícil pero una solución fácil compartir tecnología y conocimientos

qué es el acuerdo sobre el adpic pues significa literalmente aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio

podemos ver que el acuerdo fue firmado por los estados miembros de la organización mundial del comercio para proteger los derechos de propiedad intelectual

pues todo los derechos de propiedad intelectual como las patentes y los secretos comerciales

derechos exclusivos de producción uso y venta y si las empresas privadas tienen el monopolio de las vacunas contra el virus covid diecinueve no podremos vencerlo el acceso a medicamentos que salvan vidas

sudáfrica india y otros cien países piden a la organización mundial del comercio una extensión temporal sobre este acuerdo pero la comisión europea está bloqueando la petición la izquierda tanto en el parlamento europeo como aquí lucha

apoyamos esta extensión del acuerdo sobre el adpic por una sencilla razón creemos que la salud es un derecho no una mercancía

como nos preocupa que en la gestión de la pandemia tan venerada

detuviese a cinco niños de entre ocho y doce años que estaban recogiendo cardo para poder comer o como nos preocupa el juicio que están desarrollando contra el estado salvadoreño por la muerte de manuela

que no le trató la sanidad pública y que murió en prisión nos preocupan los derechos sanitarios de los y las ciudadanas de otros países y estamos dispuestas a transitar caminos para mejorar la calidad asistencial y en este caso con la vacunación contra el covid hemeretzi beraz

gracias señora presidenta sin duda alguna contar con vacunas para hacer frente

pandemia con garantías y evidentemente esto ha sido posible gracias a la colaboración público

y en efecto la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de inversión tanto en salud pública

biomédica un esfuerzo que sin duda debemos seguir haciendo

ha abierto también una serie de debates que no podemos

en primer lugar en relación a los procesos de negociación con las farmacéuticas es verdad que gracias a las negociaciones de la comisión europea contamos hoy con vacunas para nuestros ciudadanos y ciudadanas y yo creo que haber establecido un método de compra común para toda la ue ha sido positivo creo que eso es innegable mucho más cuando aún estamos

pero dicho esto es verdad que ha faltado transparencia a la hora de informar en relación a los contratos

algo que ha sido reclamado por el propio parlamento europeo y que nosotros los socialistas compartimos en segundo lugar otro de los debates gira en torno a la reversión a la ciudadanía del esfuerzo que han hecho los gobiernos cofinanciando la investigación como he dicho anteriormente con la pandemia se evidencia la importancia de la financiación

y con ello la participación de muchos factores incluidos los gobiernos en la cadena de innovación no solo en vacunas tratamientos y diagnósticos para la covid diecinueve

y nosotros creemos que la realidad del sistema de innovación actual tan ligado a la protección de la propiedad intelectual

que permitan salvaguardar el destino al interés general de toda esta inversión desarrollando otros mecanismos abiertos y compartidos de conocimiento en la lucha contra este virus en particular en la mayor parte de los proyectos existe financiación pública en diversas formas de colaboración

pero la experiencia demuestra que el esfuerzo público se diluye en el momento en que los resultados positivos transfieren a una entidad privada en muchos casos sin incluir condiciones que aseguren la futura accesibilidad y asertividad de los productos que se deriven de esas investigaciones

relativa al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

permitieron incorporar al sistema legal un marco de flexibilidades para ser utilizadas por los estados miembros de la organización mundial del comercio bajo determinadas circunstancias estos acuerdos otorgan entre otros el derecho a emitir licencias obligatorias

determinar si se conceden debido a una emergencia o circunstancias que puedan afectar a la salud de la población en este sentido a nosotros nos parece procedente trasladar a la comisión europea que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva

de posibles escenarios en los que las condiciones impuestas por las empresas para determinados medicamentos pongan en riesgo el abastecimiento de estos a todos los pacientes que lo necesiten de hecho en españa el consejo de ministros en la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del covid diecinueve recoge en su documento aprobado en julio de dos mil veinte que españa será

que se alinee que faciliten ese acceso universal y equitativo

importante trasladar a la comisión europea la necesidad de incorporar cuántas condiciones y disposiciones sean posibles para lograr precios justos así como el acceso completo a los datos fruto de las investigaciones realizadas con aportaciones públicas

debates de los que no puede sustraerse y que tienen que ser abordados

estos debates lo cierto es que necesitamos dar una respuesta inmediata

y preparar los sistemas de salud para su distribución a toda la población considerando como bienes públicos a las vacunas y tratamientos contra el coronavirus objetivo que se recoge textualmente en la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del covid hemeretzi españa es socio fundador de la iniciativa

el acceso universal y equitativo y asequible a las herramientas de lucha contra la pandemia

que se articula como el pilar dedicado a vacunas para la que se han destinado cincuenta millónes de euros a los que hay que sumar los setenta y cinco

iniciativas a las que el gobierno vasco también ha mostrado su apoyo tal y como trasladó el pasado diecinueve de febrero el lehendakari a la ministra de asuntos exteriores unión europea y cooperación arancha gonzález laya el objetivo de covax es garantizar

para finales de dos mil veintiuno que permitan acabar con la fase aguda de la pandemia según refleja la organización mundial de la salud en su documento marco para hacer una distribución justa de la vacuna

preacuerdos por hasta setecientos millónes de dosis quinientos con astrazeneca y novavax y doscientos con sanofi y gsk y está en contacto con otras compañías como pfizer

y además ha acordado con el instituto del suero de la india un compromiso para que

con destino a los países menos avanzados la contribución hecha por españa se canalizará principalmente vía el mecanismo covax tal y como recoge el plan de acceso universal

un plan que recoge principios con los que los socialistas nos sentimos plenamente identificados como son concebir la vacunación como un bien público global asegurando

un enfoque integrado el refuerzo de los sistemas de salud porque resulta esencial que los sistemas locales de salud tengan el suficiente nivel de preparación y medios para acometer la vacunación

y la transparencia seguimiento y rendición de cuentas mutua

cuenten con la máxima transparencia y permitan dar seguimiento de la correcta distribución de las mismas en definitiva los socialistas creemos que son muchos los ámbitos en los que tenemos que actuar sumando esfuerzos y voluntades para conseguir un objetivo de justicia social como es el acceso universal y equitativo

un objetivo al que nos sumamos siendo conscientes de que existe un debate abierto

pero que no nos impide actuar como estamos haciendo asumiendo compromisos concretos de financiación para contribuir a la donación de vacunas a terceros países

asequible y universal a la vacuna como un bien público global nosotros nos felicitamos del acuerdo transaccional que hemos conseguido quiero reconocer además la actitud proactiva que ha demostrado la proponente el grupo elkarrekin podemos izquierda unida

es una enmienda transaccional un acuerdo transaccional que va más allá de lo declarativo que marca un rumbo a seguir y yo creo que es un acuerdo importante
en la dirección adecuada gracias eskerrik asko rico jauna

las vacunas nos están permitiendo ver la luz al final del túnel un túnel muy oscuro y muy largo en estos últimos meses un año

nuestro día a día nuestro modo de afrontar la realidad de afrontar los problemas de relacionarnos

en general y además nuestras relaciones sociales se han visto restringidas seriamente gaur

a todo el mundo lo vemos día a día a nuestro alrededor y también lo estamos viendo a través de los medios de comunicación lo que está ocurriendo

solo mediante la solidaridad alcanzaremos una inmunidad total necesaria para ganar cuanto antes esta batalla que tanto sufrimiento está causando desde un punto de vista de justicia que todo el mundo amenazado por una patología deba tener las mismas oportunidades para prevenirla es una necesidad justa

y desde el punto de vista más práctico el mundo rico debería garantizar la vacunación del mundo con menos recursos económicos con el fin de garantizar la inmunidad total las empresas fabricantes masivas de vacunas

multinacionales que han recibido recursos y fondos de muchos países europeos para investigar y lograr una vacuna en el menor tiempo posible es hora de que los países financiadores de dichas investigaciones muestren

más pobres exigiendo a estas multinacionales farmacéuticas que provean de esas dosis a países con menos recursos

se deberían hacer a través de organismos internacionales como la organización mundial de la salud evitando de este modo mercantilistas para conseguir la inmunidad total los países más avanzados los países con más recursos deben debemos dar un paso adelante porque ayudándoles nos estamos ayudando a nosotros mismos y a nosotras mismas todo esto supone

una concertación social de los países ricos porque un reparto más amplio puede conllevar un cierto retraso en la vacunación de los países más adelantados

toda la sociedad se implique para poder alcanzar

son más alcanzables son más realizables alguien dijo que todos deberíamos

ecológico es para que no tengamos que cobijarnos

un objetivo difícil pero tenemos que trabajar para conseguirlo

confieso que no consigo acostumbrarme a estos debates que abordan cuestiones que están muy al margen de la competencia de este parlamento de este gobierno

debatimos horas sobre conflictos en los que nada podemos influir de los padecimientos de personas a las que no podemos ayudar

modifique un ápice de su particular campaña de vacunación esa que difiere del resto de españa y que impide que una mayor parte de personas tenga ya una elevada inmunidad frente a la covid hemeretzi

le pide que modifique su estrategia si es que tuviese alguna y ahora vamos a dedicar un valioso tiempo a teorizar sobre la vacunación universal el acceso a la inmunización en países pobres o en vías de desarrollo así las patentes han de ser públicas privadas o semiprivadas a lo que han de hacer las grandes farmacéuticas a las que volvemos a cubrir con la sombra de la duda a pesar de que son ellas las que están aportando algo

de aquel momento que nadie creía que iba a llegar aquel confinamiento

es más pese a la evidencia del rodillo impuesto por los partidos de este gobierno hoy pretendemos que se inste a la comunidad a la comisión a caminar en una determinada dirección escondiendo por un minuto que este es un parlamento autonómico con escasa capacidad legislativa en estos terrenos

les confieso que personalmente me encantaría que las vacunas llegasen con enorme rapidez a todos los lugares del planeta mejor que el sábado esta enfermedad sea como la definió en su día el señor simón poco más que una gripe pero la realidad es bien distinta la vacunación

y discúlpenme pero creo que son muchos los problemas que aquí están pendientes de resolución y que merecen una atención prioritaria antes de poner el foco en otros lugares

apoyar acabar con las patentes o convertir en públicas todas aquellas que no hayan sido logradas con aportación de capital público así sin más consideraciones

investigación y una última cuestión relacionada con la enmienda que han presentado los partidos del gobierno la que va a ser aprobada además por la mayoría de este parlamento

pública retorne a la ciudadanía de verdad creen que debates como este ayudan en algo a nuestra ciudadanía del país vasco

además hay que tener en cuenta que esta ciudadanía es la que está pagando este parlamento vasco por lo cual creo que había que centrarnos mucho más en todos aquellos problemas que realmente podamos

línea roja que estamos trabajando tanto en europa como aquí

y para nosotras creemos que en estos momentos dar lo que nos sobra por muy loable que sea el agente covax y encima también así lo hemos mencionado en nuestra propuesta puede acabar siendo una limosna viendo la amplitud

este serio problema sobre la liberalización creemos que tenemos mucho que hacer desde aquí o por lo menos desde el gobierno de españa ya que como está recogido en la declaración a la que se le hacía mención previamente hay que ir país por país para conocer exactamente qué mecanismos se contemplan para poder liberalizar estas patentes y a eso

valga la expresión en esta propuesta

en el primer punto el señor rico se quejaba de que la compañera saez de egilaz no se había puesto en contacto pues lo mismo les puedo decir ayer la señora gorrotxategi mandó un email la única que respondió

fue aquí la señora etxebarrieta y no ha habido ninguna otra respuesta pública por parte de nadie de los que han propuesto la enmienda de transacción nadie se ha puesto en contacto con nosotras tampoco y lo entiendo

punto entonces evidentemente ustedes están en su derecho como

estaba en su derecho de hacerlo o no hacerlo o de hacerlo con quién quería y

euskal sozialistak rico jauna bertatik zurea da hitza gracias señora presidenta yo creo que los debates

en ninguno de los dos casos nosotros no somos en ningún caso ninguno de los proponentes entonces cuando nosotros somos los proponentes y queremos llegar a un acuerdo vamos y nos dirigimos a los grupos

nosotros hemos recibido una propuesta de acuerdo del grupo proponente y en ese sentido nosotros hemos contestado punto y esa es una gran diferencia esa es una gran diferencia segundo tema que yo creo que es lo importante vivimos

y yo creo que venir a este parlamento a decir que poco nos tiene que importar ese ámbito porque tenemos cosas que hacer en el ámbito más cercano pues es no entender lo que es una pandemia

es no entender las afecciones que está ocasionando en un mundo interconectado y globalizado este virus

que hacer por un criterio de justicia social y de solidaridad porque evidentemente si nos vacunamos

a la humanidad yo creo que nos tendría que hacer pensar eso y determinadas afirmaciones que he oído aquí en la última intervención bueno pues me llevan a reafirmarme

que no están tan de acuerdo con lo que hemos transaccionado

aquí hay elementos meramente declarativos sí que no se ha incluido la chicha claro la gente suele confundir que la chicha es lo que propone uno solo normalmente

que los diferentes grupos podemos tener una perspectiva y que tenemos que tratar de sumar porque si no tratamos de sumar bueno pues las sumas dan resultados siempre los mismos siempre los mismos

acuerdo que hemos alcanzado se habla de la falta de transparencia que ha habido en la negociación de los contratos y se urge a que esos mecanismos pues adquieran transparencia y me parece importante se habla también de la reversión de la inversión pública y de cómo hay que

ante esa inversión que ha sido ingente en el ámbito de la covid

tiene que establecer los mecanismos oportunos para poder acceder a las licencias obligatorias en su caso y también para plantear cuáles son las disposiciones necesarias para garantizar la reversión en las investigaciones que haya un papel público y por supuesto

de una vacuna y decía la señora gorrotxategi y lo comparto y en el mientras tanto y en el mientras tanto los países del primer mundo yo creo que no podemos

que tenemos un deber de actuación para con los países

trasladado de forma clara nosotros apostamos por ese mecanismo de hecho es por el que está apostando

el gobierno vasco y creemos que garantizar la vacunación de esos países del tercer mundo pues es algo que nos atañe a todos nosotros

en el ámbito autonómico en el ámbito nacional por supuesto y en el contexto europeo pero el primer mundo no puede dejar de lado la obligación que tiene de considerar la vacuna de esta pandemia
como un bien de carácter universal nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak juez andrea bertatik

queda aprobada la iniciativa presentada por lo tanto pasamos al siguiente punto del orden del día

ateratako encuesta de las condiciones de vida bi mila hemeretzi ezagunean

en araba están por encima de los ochocientos euros en bizkaia por encima de los mil y en gipuzkoa por encima de los mil cien esos son los datos y esa es la cruda realidad

con los salarios y con las condiciones de precariedad que por ejemplo en el primer punto del pleno de esta mañana se estaba haciendo referencia a la precariedad juvenil pero que la precariedad

los desahucios no se han parado tampoco del todo en este

del sistema judicial y de muchos jueces y de muchas juezas en estos meses a pesar del decreto del estado de alarma donde se prohíben los desahucios sin alternativa habitacional en euskadi tenemos un ritmo mucho más elevado que en el resto del estado de creación de vivienda pública

presentado si no me equivoco esta semana y si no fue la semana anterior por parte del ministerio de transportes

en llegar a la media europea en cuanto a vivienda de protección pública aquí seguramente rascaríamos algún año

diez años menos quizás quince no lo sabemos en todo caso demasiado cuántas generaciones perdidas cuántas generaciones con problemas hasta ese momento

perfecto de precariedad laboral y de precariedad vital que se manifiesta de forma cruda en el acceso a la

etxebizitza publikoak noski seis años después de la aprobación de la ley de vivienda sigue sin estar aprobado el decreto de movilización de la vivienda vacía porque no hay ningún

para que esto sea un decreto efectivo para poder movilizar las viviendas las miles de viviendas vacías que tenemos en estos momentos en euskadi aunque bajen el suflé de las cifras en las últimas cifras de los informes del gobierno vasco hay esas treinta y cuatro mil que le decía ahora mismo el señor fernández de betoño y más de diez mil

que se podrían movilizar de forma inmediata teniendo los instrumentos que la ley de vivienda ya permite pero que

pues no lo podemos hacer y evidentemente en el tema de la vivienda es necesario

imprescindible en este momento y de una vez por todas la regulación de los precios del mercado privado de la vivienda imprescindible se hace en muchísimos lugares donde hay un mercado tensionado y es imprescindible

el gobierno vasco lo aplique con las competencias que la ley de vivienda según el acuerdo del gobierno de coalición del estado le daría para regular

paralizar todos los desahucios sin alternativa habitacional y hace escasas dos horas se acaba de realizar una rueda de prensa por parte de estos desahucios de araba solicitando a la diputación foral de araba y al gobierno vasco que

posibilidades para parar el desahucio de la familia de alegría

que sería una absoluta vergüenza que no se hiciera nada

igo gabe hamaika urte ese es el verdadero problema que tenemos es cierto se ha explicado también por el grupo proponente pues el decreto que regula la prestación complementaria

y que luego tenemos la propia ley de vivienda donde el derecho subjetivo de vivienda que por desgracia no se está satisfaciendo

prestación también reconoce esa prestación pero año tras año desde la aprobación de ese decreto y después también con la ley de vivienda

partidos del gobierno vasco y el gobierno vasco

euros a todas luces doscientos cincuenta euros insuficientes en dos mil diez la media eran ochocientos ochenta y ocho coma ocho euros el precio del alquiler y en dos mil veinte son mil treinta y cuatro y bastante bastante diferencia y también

suministros por tanto en este caso volvemos a pedir audacia más política pública más presupuesto y por supuesto también regular el precio

es urgente es urgente aumentar la prestación complementaria de vivienda y la prestación económica de vivienda desde los doscientos cincuenta euros hasta los trescientos euros

doscientos cincuenta euros pregunto cuánto ha subido el precio del alquiler de las viviendas en euskadi en diez años cuánto ha subido la vida en euskadi en los últimos diez años se puede afirmar aquí

del dos mil diez son los mismos doscientos cincuenta euros que en el año dos mil veintiuno señor arriola

sea más ambicioso que acelere porque es importante y urgente subir las prestaciones para garantizar unas mejores condiciones de vida a las personas que tienen su derecho

parcialmente concedido con estas prestaciones que no llegan para garantizar unas condiciones de vida adecuadas eskerrik asko eskerrik asko

iniciativa de eh bildu nosotros creemos conveniente una vez más ir al fondo de la cuestión y para nosotros el fondo de la cuestión es sin duda ir al marco

las referencias que tienen que ver con el empleo con el servicio vasco de empleo y con el sistema de protección en euskadi que por un lado

social modificada en el año dos mil once

de lanbide el servicio vasco de empleo que como he dicho en mi primera intervención en el primer punto de este pleno

en su integridad en su totalidad para convertirse en lo que no es ahora un verdadero servicio de referencia para los ciudadanos vascos es decir lanbide se tiene que convertir que es lo que no es ahora en un verdadero servicio de referencia en la búsqueda de empleo para los ciudadanos vascos consideramos por lo tanto que se tienen que cumplir los compromisos

consejera en su momento la señora artolazabal señaló en materia de las políticas de empleo como son la reforma de lanbide del servicio vasco de empleo y de la legislación que regula el sistema de protección en euskadi y no fue así y en este sentido deben de ser como digo y mantenemos

estas cuestiones las que tienen que ocupar un lugar destacado en las políticas que tienen que poner en marcha ya

las reformas de estas dos materias nosotros también entendemos que tenemos que configurar un sistema justo de servicios sociales

a que en el sistema de servicios sociales las ayudas sociales las reciban aquellas personas que las tienen que recibir y que no haya abusos

que atengamos situaciones de especial necesidad que en este momento no están en el sistema yo hace poco llevé una iniciativa para que las personas

lo había decidido el gobierno vasco con una interpretación distinta de la normativa vigente

la normativa para que estas personas que no tienen otros recursos no tienen recursos de otro tipo

instituciones forales pues pudieran así acceder a una vivienda porque es el único instrumento

a una vivienda por otra parte que no se compute creo que eso también hay que atenderlo en

un trastero o alojamientos de este tipo pequeños que sin duda no se computen como una vivienda y que están haciendo que mucha gente especialmente mayor y en una situación de necesidad no puedan

pero también como decía pues hay que atender las disfunciones que también produce

en euskadi como decía finalmente instar al gobierno vasco también a la reforma

no es un servicio de referencia un servicio eficaz en la búsqueda de un empleo y eso es lo que también debe de ser una acción principal de este gobierno para que efectivamente pues sea un servicio de referencia y eficaz en la búsqueda de un empleo

bueno este tema se podría abordar también en el marco de estas dos

que yo señalo especialmente también en la reforma de la ley que regula las prestaciones económicas

pero creo que no es adecuado hacerlo a través de la iniciativa que se ha propuesto y por otra parte hombre también quiero recordar y en ese sentido creo que también lo destacarán los grupos que apoyan al gobierno pero creo que es una cuestión que hay que destacar que esta misma semana se ha incrementado la partida de las ayudas de emergencia social que como todos sabemos es una partida

subjetivo que presenta la renta de garantía de ingresos pero que sirven para atender situaciones de necesidad que tienen que ver con el alquiler amortización de créditos energía

y algunas otras cuestiones en ese sentido la partida de las ayudas de emergencia social

por lo tanto creo que también aquellas necesidades de especial vulnerabilidad o aquellas situaciones de más necesidad que han podido aflorar con la crisis

está afectando a muchos vascos también se puede paliar de alguna forma con este incremento de las ayudas de emergencia social pero repito para nosotros constituye una prioridad

haga ya de una vez por todas los deberes y que aborde sin dilación tanto lo que es la reforma

en cuanto a la enmienda de transacción obviamente no la apoyaremos y nos

posible egiten duena pero antes de navegar en otras aguas considero que conviene

que en pocas ocasiones solemos realizar que es poner en valor lo que tenemos y relatar lo que tenemos los socialistas no solo queremos que se incrementen las ayudas queremos que se incrementen los derechos y no solo lo décimos como en este caso ya que la enmienda correspondiente lo afirmamos claramente sino que lo hacemos

y de lo otro gracias a que hacemos hay precisamente una ley de vivienda única en españa

y por su seguridad jurídica una ley pionera y valiente porque los socialistas abrimos ese debate en un contexto de crisis cuando precisamente más era necesaria

porque supimos sacarla adelante con dos partidos antagónicos eh bildu y

con la participación de numerosos agentes un proceso participativo que dicho sea de paso ha sido premiado por la onu una ley que también dicho sea de paso a día de hoy nadie cuestiona y todos reivindican a pesar de que en aquel momento algunos renegaran de ella

este gobierno de coalición en la parte que lideramos los socialistas tiene como objetivo prioritario

sus principales políticas amén de otros programas como pueden ser

debe descansar sobre el concepto de aseguramiento del alquiler asequible y la contribución efectiva pública a ello sin amparar ni promocionar o consolidar situaciones

que con determinadas políticas pudiera suceder a nivel europeo existe una amplia variedad de criterios y definiciones sobre lo que es vivienda asequible el hecho de que no haya precisamente una definición oficial legal o estatutaria del término vivienda asequible

y evaluación sistemática de las iniciativas de política de vivienda a ese nivel ahora bien la medida más utilizadas es la de medir la asequibilidad de la vivienda en base a la relación

o los hogares la práctica habitual en la que se basa la mayoría de las políticas de vivienda es la de considerar que los hogares no deben gastar más del treinta o el cuarenta por ciento de sus ingresos

como la proporción de la población que vive en hogares que gastan el cuarenta por ciento más de su renta disponible equivalente

en dos mil dieciocho el diez coma dos por ciento de los hogares de la unión europea gastaban el cuarenta por ciento más de sus ingresos en la vivienda esté sobreesfuerzo del gasto es un problema

y algo menor en el caso de la población inquilina de vivienda social a precio reducido y especialmente menor

hipotecas en tanto en cuanto no se desarrolle normativamente el derecho subjetivo en el que precisamente está trabajando intensamente

la ciudadanía en euskadi cuenta con otras garantías cosa que dicho sea de paso también es otra cualidad del gobierno de coalición

de la situación no es ajeno a la realidad que estamos viviendo por ese motivo ha analizado concienzudamente esta cuestión y en estos momentos creo que podemos decir sin ánimo a equivocarnos

al presente año las ayudas excepcionales derivadas del covid para el pago del alquiler libre

nos hace pensar que hemos sido capaces de dar respuestas inmediatas ante la peor

y economía dicho sea de paso dos ayudas las excepcionales derivadas del covid para el pago del alquiler libre y el refuerzo en el caso de las aes más destacado

ni por el grupo proponente ni con el grupo al que ha alcanzado una transacción porque miren cuando este gobierno no puede garantizar una vivienda en alquiler a quienes necesitan vivienda se les da cobertura

con otros recursos recibiendo así la protección de su gobierno en euskadi más de la mitad del total del parque en alquiler está intervenido por el gobierno vasco o bien por las ya casi veintiséis mil viviendas de promoción pública en alquiler o bien

y eso ese elemento esto es lo que precisamente nos diferencia con cualquier otra comunidad autónoma de cualquier signo

en las clasificaciones positivas que precisamente importan no en otras superficiales algunas de las cuales han sido las que se han mencionado en esta

la existencia de ese aseguramiento social viene precisamente porque hay unos presupuestos garantizados en este caso gracias a la estabilidad institucional que dota de una mayoría representada en esta cámara de la mano del partido socialista de euskadi y del partido nacionalista vasco

es el reglamento del derecho subjetivo a la vivienda quien puede y debe desarrollar una actualización de las prestaciones al alquiler de vivienda con efectos para el dos mil veintidós

dirigido a acompañar al gobierno en el trabajo que está desarrollando en la culminación de dicho reglamento es más dicha cuestión está perfectamente blindada en la ley de presupuestos actualmente vigente más concretamente en la disposición adicional séptima en sus actuales términos garantizando que el diseño definitivo del derecho subjetivo a la vivienda

en un futuro hubieran podido ser o que hayan sido perceptores de la prestación complementaria de vivienda queden sin derecho a percibir la prestación económica de vivienda y asimismo asegura una transición ordenada y garantista de uno a otro sistema en cumplimiento del acuerdo en esta materia del parlamento vasco aquí aprobado

en base a los objetivos previstos en cualquier caso la dotación de gastos ampliable en función de necesidades al ser un derecho subjetivo

de dos mil veintiuno en su punto diecinueve cuestiones estas

fue el grupo que presentó enmiendas al respecto de la cuestión que hoy nos ocupa el departamento competente

dando cumplimiento al acuerdo parlamentario de dos mil diecisiete mantiene una línea de trabajo coordinada con lanbide con el objetivo de realizar un traspaso ordenado entre ambas prestaciones al alquiler

en el desarrollo de una ley y de unas prestaciones en la que algunos podemos decir alto y claro que tenemos mucho que ver en tanto en cuanto fuimos nosotros

que la ciudadanía vasca cuente con una ley que ampara un derecho el de tener un techo digno en el que vivir a través de políticas efectivas que no dejan a nadie atrás eskerrik asko

iniciativa y suele pasar cuando hay presupuesto de por medio por parte cuando hacemos propuestas desde los partidos que estamos en la oposición

realista que compartimos pero porque compartimos porque ya habíamos hecho

la negociación presupuestaria y las enmiendas a los presupuestos y además el cálculo que habíamos hecho era similar al que había hecho el señor fernández de betoño y

dispuestos y dispuestas a negociar cuál puede ser el cambio del método de cálculo qué índice se utiliza pero es que no decís absolutamente nada de eso en la enmienda que vais a aprobar en el día de hoy podía haber sido una subida basada

no tiene que tener efectos retroactivos bueno podemos entenderlo a partir de que se apruebe aquí y se introduzca en el decreto pero por qué algo de lo que valían en enero de dos mil veintiuno

ahora que es once de marzo no vale

coger el decreto del ministerio de transportes y haber dicho bueno pero la subimos a novecientos euros

no hemos hecho eso hemos dado una cifra realista en base al incremento de los precios durante once años que no estamos hablando de ayer once años de incremento de precios del alquiler del ipc del precio de la vida

cuarenta y tres coma cincuenta porque es el índice que hemos acordado utilizar bueno hagámoslo pero se ofrecieron veinticinco euros ha dicho por lo menos ese margen sabemos que hay ese diez por ciento eso es lo que queríamos con la iniciativa de y con la transacción de hoy claro se apela y se ha apelado

se vuelva a hacer pero bueno hubo una enmienda parcial que se podría haber acordado también como se hace en los ayuntamientos o como se hace en otras instituciones esa opción estaba encima de la mesa que tenga que llegar con el decreto sí bueno pero es que llevamos esperando cuántos años ese decreto cuánto tiempo más vamos a tener que estar esperando a ese decreto y luego corríjanme si me equivoco

al gobierno y es una proposición no de ley de impulso a la acción del gobierno

no sé en el día de hoy pero en infinitos en infinitos acuerdos se ha instado al gobierno a que en el decreto equis

equis modificaciones por tanto opciones había no hay voluntad en este momento seguramente porque no interesará llegar a un acuerdo en este momento o porque

ustedes lo explicarán pero que había margen lo sabemos porque está negro sobre blanco en documentos del gobierno vasco que al menos el margen en el año dos mil veintiuno

las prestaciones de vivienda estaba y la enmienda parcial estuvo

la confianza política no se hace en cuarenta y ocho o setenta y dos horas y no se hace sobre todo después del recurso del gobierno vasco por ejemplo

para una enmienda parcial podíamos ponernos de acuerdo y no quisieron eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea yo voy a reiterarme ustedes

el resto de cuestiones de prestaciones de refuerzo de las ayudas existentes derivadas del covid que ha hecho este gobierno

entonces ustedes aquí a qué han venido en fin los señores de elkarrekin podemos ahora han escurrido el bulto ustedes podían haber negociado una subida

pero dijeron que lo suyo o nada para ustedes negociar es eso o lo suyo o nada y eso no es negociar eso es imponer y aquí no estamos para imponer estamos para negociar

supuestamente de gobierno como ustedes no sepa que hubo unas medidas extraordinarias aprobadas por un gobierno en el que ustedes forman parte

limita notablemente la posibilidad de llevar a cabo determinados desahucios

le puedo decir que a día de hoy a día de hoy durante este año el número de desahucios que se han producido no son ni la mitad que en años anteriores

pero póngalo entre otras cosas por favor poniéndose un poquito en valor con lo que ustedes hacen en otros

porque hay una ley saben por qué hay una ley porque los socialistas lo hicimos y fuimos capaces de aprobarlas ustedes formaron parte de otros gobiernos anteriores y fueron incapaces de hacerlo

en la exposición de los presupuestos del señor arriola si tan claro lo tenían por qué no presentaron una enmienda lo podían haber hecho pero claro ustedes hacen políticas de titular no hacen políticas reales ustedes vienen aquí a hacer políticas de titular y no a ofrecer posibilidades reales de hacerlo por qué no presentaron una enmienda

negociar con ustedes algo relativo a una ley que ustedes apoyaron podían haberlo hecho no lo hicieron en cualquier caso a ustedes no les gusta el mercado privado

los datos que nos traen aquí son los de un portal que se dedica precisamente al mercado privado cualquiera les entiende en cualquier caso han venido a hacer un análisis de mercado sin importarles precisamente ni las políticas de protección ni las políticas en materia de vivienda que hace este gobierno si quieren hacer un análisis

encima de la mesa y para colmo ustedes vienen diciendo que bueno que idealista dice que el precio de la vivienda ha subido un diecisiete por ciento pero que ustedes redondean y suben

la propuesta que hacen eso qué alimenta precisamente puede alimentar el incremento del precio en el mercado

ustedes mismos también son incapaces de poner en valor una ley de la que son partícipes porque ustedes también la negociaron ustedes también

se dedican a imprimir pancartas para enseñarlas en este estrado nosotros nos dedicamos a imprimir boletines oficiales que traen políticas efectivas

bueno buenos días gracias presidenta las explotaciones agroganaderas es decir las agropecuarias y ganaderas son parte de las actividades materia laboral y sanitaria se resienten cuando les afecta

obligatorias del covid y tareas como el ordeño de vacas alimentación del ganado uso de maquinaria para la siembra o roturo pueden ser suplidas por personas formadas en centros formativos para realizar estas labores mientras los titulares de la explotación están pasando la para entera obligatoria por covid o simplemente necesitan ser sustituidos en un momento puntual la

perjuicios en un ciclo productivo agroganadero en muchos casos son superiores

por ello en aras a asegurar el nivel de actividad necesario

una vez tenga el personal recuperado cada territorio tiene una casuística distinta por el tipo de explotaciones las de álava no tienen nada que ver con las de gipuzkoa o bizkaia aunque las de

no tiene nada que ver pero lo que sí tienen en común es que a los animales hay que cuidarlos todos los días y la siembra tiene un periodo adecuado

dejar para más tarde ciertas acciones en este sector y

no de ley para atacar estas carencias necesitamos personal en la recámara formado y solo si lanbide trabaja para generar recursos cursos de formación en estos sectores y solo si las diputaciones participan en esa bolsa de trabajo generada por lanbide

y formados para desempeñar las tareas necesarias para que las explotaciones

no pierdan su ciclo y esto va en el sentido de mantener nuestro sector primario

el kilómetro cero ha ganado peso y debemos conservarlo tienen un impacto positivo

donde hay explotaciones hay repoblación hay cuidado del medio ambiente lo decíamos el otro día

para que nos aclaremos y voy a hablar de cifras tenemos

ovino caprino porcino aves la mayoría

por lo tanto siguen siendo explotaciones pequeñas pero no son menos importantes están dentro de lo que es

y se nos llena la boca hablando del sector primario del impulso de este sector

que no estábamos preparados en ningún sentido por eso tenemos que afrontar los cambios

con esta pandemia y hoy con esta iniciativa

fomentar impulsar la formación de trabajadores que estén en disposición de incorporarse en cuanto se les necesite para acudir a trabajar a las explotaciones que lo necesiten me repito

en cada territorio por tanto lo que proponemos es formación y coordinación formación por parte de lanbide coordinación por parte de la diputación con respecto

y quiero ser muy breve pero no quiero cesar mi vehemencia el sector primario es importante

de cuidar para su persistencia es un sector que aparte de abastecernos de darnos ese círculo

que nos cuida es necesario en estas tierras cuando se dice en una comisión que cuidan nuestros montes porque los agroganaderos pequeños son los que saben perfectamente

ellos son los que necesitan apoyo y ha quedado demostrado que no tenían apoyo y que no lo tienen que vamos de boquita pero realmente necesitan un apoyo real y soy consciente de que no se puede hacer la casa por el tejado y que un primer paso

empezar a formar a jóvenes o a gente interesada en el sector para que puedan sustituir

a los titulares de las explotaciones cuando tienen necesidad para luego quizás pasar a formar parte de esas plantillas pero es importante

pero que empecemos a hacerlo realmente y he sido muy breve pero creo que la intensidad de mi discurso es suficiente como para que todos entiendan que es necesario

estaltzeko laguntza lerro bat ezartzea beharrezkoa dela me gustaría enumerar algunos de los problemas más frecuentes y la solución que desde la administración se ofrece en la mayoría de los casos

solución subvenciones inundaciones sequía plagas enfermedades subvenciones

subvenciones inversiones imposibles de asumir para adaptarse a las interminables listas de requerimientos de producción y medioambientales

subvenciones y hoy que planteamos un servicio de sustitución para vacaciones bajas etcétera

veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año es así es una labor esencial y aunque cuando hablamos de cuidado nos referimos a otra cosa nos referimos a los cuidados de las personas

de animales pero los animales tampoco pueden dejarse para el día siguiente tampoco se desconectan deberían garantizarse como en otros sectores los servicios mínimos pero no están garantizados y si no hay relevo es porque hay poca gente que quiera trabajar en el sector y que quienes quieren

con este panorama nos encontramos de entrada con dos cuestiones que mejorarían notablemente con la puesta en marcha de un servicio de sustituciones en primer lugar la calidad de vida de las personas que trabajan en el sector

y por desgracia se ponen enfermas como todo el mundo y sufren accidentes como todo el mundo y aunque parezca que se asume lo contrario merecen descansar y desconectar de vez en cuando como todo el mundo el servicio de sustituciones debería hacerlo posible en segundo lugar también se facilitaría el relevo la mejora de la calidad de vida de estas personas que trabajan en el primer sector traería que este fuera más atractivo

además con la creación de una bolsa estable de personal bien preparado sería posible que las personas que no tengan acceso

se podrían buscar fórmulas de cooperación arrendamientos traspasos contratos de relevo

estaríamos creando empleo que no se nos pase por alto creando empleo

es una oportunidad que no deberíamos dejar escapar por otro lado desde las explotaciones se acogería con tranquilidad a las personas que vinieran a realizar la sustitución ya que se trataría de personal formado preparado

porque es difícil recurrir a este servicio si no se tiene confianza suficiente en que quien va a venir a realizar la sustitución

no vale cualquiera el personal que acuda a las explotaciones debe estar formado

para conocer el manejo y es imposible contratar una sustitución teniendo en cuenta la escasa rentabilidad de las explotaciones familiares

estamos hartas de denunciar que los cuidados no están debidamente reconocidos ni debidamente remunerados este modelo de sociedad este modelo de bienestar descansa sobre esa injusticia del mismo modo estamos asumiendo que a las personas que trabajan en el primer sector no se les remunere decentemente

por las interminables jornadas y los calendarios sin descanso alguien se lo ha planteado sin embargo nos parece normal que ni cobren lo justo ni descansen lo necesario ni puedan parar cuando están enfermas

la iniciativa que nos ha presentado la señora larrea es una iniciativa que tiene

que efectivamente va a un problema del que se viene tratando desde hace mucho tiempo y para el que existen distintos comportamientos y soluciones en el país vasco es cierto que las explotaciones agroganaderas tienen algunas

y algunas fórmulas de tratamiento en relación a que o bien sean los titulares de las explotaciones los que puedan ejercer

ese derecho a subvención o bien sean asociaciones que intervienen y que regulan

hay una situación diferente no existe esa ayuda

tiene rasgos diferenciados fundamentalmente en cuanto a la expansión en unos territorios hablamos

familiares a veces con un solo titular en otros lugares en concreto en álava estamos hablando de explotaciones más amplias y algunas de ellas

estamos hablando de otras necesidades y de otra forma de interpretar el trabajo en la agricultura y en la ganadería

que en la agricultura falta mano de obra y de hecho

es necesaria la contratación de trabajadores y además de trabajadores de fuera del país vasco porque no hay bolsas de trabajo en el país vasco para atender esas necesidades y es cierto que para la ganadería que hay es una mano de obra intensiva de una dedicación plena

pues también existe dificultad para encontrar y para poder encajar a trabajadores no hay no hay bolsa de trabajo

y esto es lo que nos lleva a la raíz del problema es cierto que la iniciativa partía de una referencia a la situación generada por el covid es cierto que también al tiempo en el que estamos viviendo el momento de la pandemia pues afortunadamente vemos

de ella por tanto en el tiempo que se pudiera precisar para formar trabajadores y para poder derivarlos a las explotaciones agroganaderas seguramente

la vacunación por lo menos con ese criterio sanitario y político se trabaja y por eso quizás había que

a un aspecto muy concreto al problema de la formación en el sector y las bolsas de trabajo o incluso en la gestión de esta propia formación y de esta propia colocación de esos trabajadores

interés social porque puede crear puestos de trabajo y estamos ante un espacio que luego necesita una gestión específica porque va a ser un trabajo con temporalidad y va a ser un trabajo con mucha movilidad porque si hay que atender periodos de vacaciones hay que atender periodos de bajas hay que atender periodos muy

obviamente eso no generará una estabilidad laboral en un sitio fijo pero sí lo puede crear en un radio

en movimiento y precisamente por eso necesitamos que haya una formación que haya bolsas de trabajo y que además estas luego puedan ser gestionadas de tal manera que los trabajadores de la bolsa más o menos puedan estar trabajando de una forma estable aunque estén sujetos a una movilidad y a un cambio incluso de actividad de trabajo concreto

creando por eso en la iniciativa de la señora larrea que es una iniciativa que ya digo tiene interés y que lo compartimos no solamente desde el espacio público que significa este parlamento o el gobierno sino también desde las diputaciones forales y por supuesto desde el sector agroganadero he tenido la oportunidad en relación a este asunto de hablar con asociaciones agroganaderas y efectivamente comparten la necesidad de esa formación una formación que razonablemente se debe

desde la formación para el empleo que se puede hacer desde el propio gobierno vasco en colaboración con las diputaciones forales evidentemente porque son las que tienen más competencias en lo que es el funcionamiento del propio sector pero en esa de encuentro estamos por lo tanto creo que hemos habilitado mediante la enmienda transaccional una fórmula que puede ser muy interesante para el empleo para la actividad económica y para la atención

un sistema de respiro para poder no solamente

tener una vida social atender a su salud y atender a muchas más cosas es cierto que cada vez sobre todo donde el problema es más grave en las explotaciones familiares las familias están dotadas de menos miembros y cada vez hay menos miembros de esas familias más pequeñas que quieren dedicarse a la agricultura y a la ganadería es necesario incentivarlo de alguna forma darle algunas expectativas y algunos alicientes para que el trabajo pueda permitir también la vida social y la enmienda transaccional va en esa línea en esa filosofía
y esperemos que a partir de la aprobación en este parlamento se ponga en marcha muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

kezken eraginpean baina baita indar eta aukera handiekin ere la mayoría de las explotaciones son familiares y presentan algunos problemas como el relevo generacional

que requiere atención diaria por parte de los agricultores y los ganaderos y hablo en masculino porque otro de los retos a los que debe hacer frente el sector primario es el de la visibilización

hay muchas mujeres que gestionan caseríos que generan productos de gran calidad con el cultivo de sus tierras y el cuidado de sus animales y que comercializan y distribuyen esos productos por tanto hay que otorgarles el papel que merecen y facilitar e impulsar la incorporación de más mujeres

durante la pandemia fueron reconocidos como sector esencial y respondieron a la demanda

es un sector al que debemos agradecer su trabajo que insisto es continuo no conocen las jornadas de ocho a tres ni los puentes ni los festivos y si algo bueno ha traído esta pandemia es que ha puesto en valor el producto local el kilómetro cero los productos de nuestros baserritarras y la

cada día cobran mayor importancia porque son productos de calidad y cercanos con una trazabilidad que genera confianza la sociedad cada vez valora más que los alimentos que

incluso los y las turistas que nos visitan muchas de esas personas lo hacen por nuestra gastronomía

se le está dando más importancia y se tiene muy en cuenta el origen de estos productos por eso consideramos que este cambio nos ofrece una gran oportunidad y que hay que aprovecharla y ahí estaremos apoyando al sector para que produzca con mayor calidad y sostenibilidad eta lan hori guztion artean egin behar dugu

pero también hay que reconocer que es un sector en el que mucha gente no quiere trabajar precisamente por lo que he comentado

y eso pasa por la especialización mediante la formación solo así sus trabajadores y trabajadoras tendrán calidad de vida dignificar es intentar generar buenas formas de trabajo porque para hacer atractivo el sector y que las personas quieran trabajar en él hay que dotar de calidad de vida a esas personas

porque estamos hablando de un sector que tiene necesidad de mano de obra pero no resulta atractivo y por otro lado

como se ha comentado aquí sabe trabajar con animales ni ordeñar ni podar y ningún titular de explotaciones quiere que sus empleados o empleadas no sepan desarrollar sus tareas todo lo contrario

por eso apostamos por la formación porque es necesaria hoy en día para desarrollar las diversas tareas que hay que llevar a cabo

las necesidades específicas que demanda el sector y que genere confianza entre las personas que van a desempeñar las labores y entre los y las titulares de las explotaciones solo así se logrará mayor valor añadido profesionalizando el sector generando empleo y facilitando la fijación de población

pero hacer atractivo el sector y modernizarlo también pasa por la reforma de la pac y para ello es esencial contar

diseñado desde el consenso entre los agentes implicados porque la defensa de los intereses del sector se tiene que hacer desde la colaboración y la cercanía

cada vez más habitual este servicio de sustituciones que ofrecen las diputaciones bien es cierto que en álava no está funcionando actualmente porque no hay demanda no por ningún otro motivo

a todas las personas que lo solicitan los recursos se deben adaptar a las demandas y a las necesidades

con respecto a la situación concreta de covid durante la pandemia se ha adaptado el programa de temporerismo a la situación sanitaria

y fue posible gracias a la colaboración entre gobierno vasco el departamento de salud

y por eso nuestro grupo entiende que se debe ir más allá del covid porque para esta cuestión concreta ya se han dado respuestas concretas y la pandemia en algún momento terminará pero las necesidades seguirán ahí

una enmienda transaccional con el grupo popular ciudadanos en la que instamos a todas las instituciones competentes y a los agentes implicados a que orienten a personas trabajadoras en la búsqueda de empleo

a través de acciones de formación especializada e intermediación con las explotaciones demandantes con el fin de disponer de personas interesadas en su incorporación laboral a esta actividad

lograr la inserción laboral de personas a un sector que necesita mano de obra y como decía además

de la situación de la pandemia actual eta bukatzeko bueno larrea andreari eskerrak eman nahi dizkiot gurekin

gracias señora presidenta buenas tardes señoras y señores parlamentarios en primer lugar decir que voy a ser muy breve porque en las diferentes intervenciones que me han precedido han dejado ya muy clara cuál es la problemática y la situación a la que está abocado nuestro sector primario

de que la iniciativa que ha traído a esta cámara para mí es muy acertada

pero poco hemos analizado realmente el complicadísimo día a día en explotaciones agrícolas y ganaderas dos sectores fundamentales para toda la ciudadanía por ser parte

en tiempos de cosecha supimos que hubo serios problemas para la contratación de temporeros a pesar de que el campo no espera y sus tiempos nada entienden de pandemias y hemos escuchado a algunos observar preocupados el futuro ante el riesgo de contagiarse y no tener a qué agarrarse para garantizar la producción y el futuro de sus empresas

pasa por el interés que genere en las nuevas generaciones y por supuesto por la disposición de trabajadores formados para mantener una actividad esencial dicho esto como ya le he dicho vemos con muy buenos ojos la propuesta del grupo popular ciudadanos y además es

y también vemos muy bien la transaccional que han firmado con los diferentes grupos del gobierno por lo cual les diremos que apoyaremos su iniciativa gracias eskerrik asko martínez andrea

en primer lugar sí que reconocer la oportunidad del debate efectivamente

de hablar de la realidad de los agricultores en relación con la

fruto del covid que ese básicamente era el motivo original de la iniciativa planteada por la señora larrea es verdad que los datos del sector agroganadero son dramáticos ha sufrido mermas muy importantes tanto por la covid como por otras

explicado tanto cuestiones que vienen ya siendo estructurales como la dificultad en el cambio

como también por situaciones más globales como los aranceles entre estados unidos y europa recientemente eliminados de manera temporal pero en cualquier caso los datos son los que son se ha registrado un recorte

añadido de este sector del veintiséis coma tres por ciento respecto al trimestre del año anterior y del quince coma tres en relación al tercer trimestre del año son datos dramáticos del descenso del sector y además creemos que probablemente la tendencia

esta realidad cuanto antes pero yendo a la circunstancia extraordinaria del covid y la situación que viven los agricultores o ganaderos la realidad y aquí se ha mencionado es que estos y estas no pueden teletrabajar ni pueden negociar un erte

tampoco pueden contratar a personas que las sustituyan porque los números no dan una gran empresa bodeguera o una multinacional probablemente sí puedan hacer uso

por otro o por otra pero los baserritarras autónomos o con negocios familiares en muchas ocasiones

con estos sobrecostes que no olvidemos son para contratar a personas que les sustituyan mientras están de baja médica debido al covid este era el sentido original de la propuesta es verdad que ha devenido finalmente una transaccional

de acciones en favor de o mecanismos para orientar en la contratación de personas que vengan a sustituir a las que vivan estas situaciones dramáticas en el futuro ya una vez pasemos el covid

normalizada creemos que la verdad es que es diluir en gran medida el espíritu original de la propuesta creemos que no a hablar en ningún caso de prestaciones directas de ayuda

a estos colectivos como sí se menciona por cierto en la enmienda de eh bildu creemos que es

una pérdida en el proceso negociador que hayan tenido y en su caso pues motivo por el cual nosotros

sí pensábamos tener una posición favorable respecto a la original del partido popular aun considerando que le faltan muchas cosas que creemos que la enmienda planteada por eh bildu en relación tanto con las bolsas de empleo como con las líneas directas de ayuda en el caso de sustituciones aborda mucho más de lleno lo que tiene que ver con la casuística de la problemática de los baserritarras y las baserritarras

el gobierno vasco además de en este sector tanto en otros no aborda con ayudas directas ni con la necesaria aportación económica

de extraordinario o extraordinaria precariedad y falta de

en plena pandemia nos parece lamentable que las ideas y fondos millónarios sean por lo general para multinacionales saneadas o en su defecto como hablábamos el otro día en un pleno de control para el corredor de hidrógeno o para empresas en crisis como

millónarios de facturación y no así en casos como los que estamos mencionando ahora mismo que no se aborde con la valentía necesaria ayudas directas al sector en el caso de las sustituciones

en lo que tiene que ver con las ayudas directas a los agricultores y ganaderos que necesitan contratar a personas para sustituirlas por estar de baja por covid por eso apoyaremos

con condicionantes es decir siempre hemos hablado de que se perciban ayudas directas condicionadas en su caso al mantenimiento del empleo o a determinadas

por empresas agrícolas de gran

en su facturación nos parece además adecuado la necesidad de crear las bolsas de trabajo

y de formar que sí que es cierto que eso en la transaccional figura formar a personas para trabajar en explotaciones agroganaderas siendo necesario para ello la colaboración entre el sector primario y lanbide

creemos que el gobierno vasco podría hacer uso de hecho del fondo covid que estableció en sus presupuestos para atajar la situación que se vive en relación con este sector y hacer uso de esos recursos para plantear ayudas directas en el caso de la necesidad de sustituciones y no

hablar de este tema en esta sede parlamentaria aparte de los problemas estructurales que tiene el sector agroganadero con respecto al mantenimiento de sus explotaciones porque

quiero decir que agradezco la voluntad de los grupos que han aceptado la transacción porque se trata de partir de unos máximos intentar llegar a acuerdos y eso es lo que hemos intentado con esta llegar a acuerdos para poner el primer pie y la primera base para

realmente y tendrá a futuro necesidades de que volvamos a retomar el tema

concreta a las diputaciones forales y a los representantes del sector ganadero y ha acabado firmando una transaccional con los grupos que sustentan al gobierno sin ninguna concreción instituciones competentes y los agentes implicados tan complicado es decir de quién estamos hablando

en su incorporación laboral a esta actividad dónde hay que dar servicios de sustitución señora larrea porque no es lo mismo

totalmente vacío se limita a cubrir el expediente para que parezca que se hace algo mientras se deja todo exactamente igual pero lo suyo sinceramente no lo entiendo porque una cosa es renunciar a algo y otra cosa es olvidarse de la iniciativa que se ha presentado y firmar una declaración totalmente hueca

y tratar de llegar a un acuerdo cuando sabe perfectamente que en otras instituciones se ha llegado a un acuerdo con nosotros y con otros grupos con un contenido bien distinto

de lo que dijo su compañero en juntas generales de araba en juntas sí y aquí no

la intervención de su compañero la ha escuchado la transaccional se la ha leído

primer punto servicio de sustitución gratuito y tramitado telemáticamente segundo punto

por enfermedad o accidente y maternidad o paternidad tercer punto colaboración con lanbide uaga y abere para acompañar

parecido no no sé en qué se parece esto a lo que ha firmado usted hoy

y hoy siento decirlo le han ganado la partida están frotándose las manos no era de los grupos la iniciativa era suya

y pierden las posibilidades de relevo y pierde el desarrollo rural

ha quedado como siempre en palabras así que
como es lógico votaremos en contra y defenderemos nuestra enmienda eskerrik asko eskerrik asko

presidenta yo diría que el acuerdo es importante

coger distintos caminos se puede hacer la política de gestos

o se puede hacer una política más pragmática llegar a acuerdos

y tratar de poner remedios es precisamente lo que no partiendo de ahí

de la señora larrea porque efectivamente en ese intercambio de opiniones hemos comprobado que el problema no está en hacer una disposición por la cual se habilite una línea de crédito para que aquellas explotaciones agroganaderas que necesiten sus titulares

puedan tener una financiación sino que el problema y basta con tocar la tierra

toca mucho la tierra basta con hablar con

agricultores y ganaderos que en concreto en álava planteaban para qué queremos una línea de subvenciones para contrataciones

no se ha pretendido seguir el recorrido de otra iniciativa de juntas generales de álava que tenía un componente publicitario que es lógico de los grupos de oposición ciertamente en álava se hizo el debate por la parte de la oposición en los términos que usted ha señalado

de los grupos tampoco se quedó en y tampoco pasó a formar parte

a lo que termina siendo una opinión

y este es el espíritu del acuerdo si no tenemos

agroganaderas qué hacemos pues tenemos que buscar personas que estén dispuestas a formarse

en un sector que tiene su complicación y además a ofrecerle un tipo de trabajo en el que la continuidad hay que gestionarla porque es para espacios

dentro del territorio y entre territorios es decir nada fácil y de hecho como todo el mundo sabe

en el país vasco es necesario que vengan trabajadores de otras comunidades autónomas

la iniciativa tiene en su resultado final su peso y su importancia porque

a un sector económico pero también afecta a una oportunidad de formar para crear directamente puestos de trabajo y para que estos puedan ser gestionados en las explotaciones agroganaderas por tanto en el parlamento hoy sí se está dando un paso con un compromiso interinstitucional entre el gobierno que sabe que tiene la actividad de la formación para el empleo

y las diputaciones forales que son las que tienen que entre todos organizar esta formación estas bolsas de trabajadores y esta gestión posterior de los trabajadores si uno mira

a este respecto no está la figura de covid pero están todas las demás

matrimonio en fin por otro tipo de cosas ya existe y si se fijan en las dotaciones las dotaciones digamos que no son para echar cohetes

es un problema de disponibilidad de trabajadores y para eso lo mejor es hablar con las organizaciones

y se lo explicaran muy bien y verán cómo está en la línea de lo que estamos acordando hoy

cuando planteamos la enmienda la planteamos como un impulso de inserción laboral para ayudar al sector es decir vamos mucho más allá y consideramos que el acuerdo al que hemos llegado es un buen acuerdo porque la iniciativa original hablaba de un tipo de sustitución concreta y además es que el servicio de sustituciones ya se está ofertando es que lo he comentado en mi primera intervención lo ha comentado el resto

funciona perfectamente en álava se eliminó por falta de demanda porque no había demanda por lo tanto si no hay demanda dónde está el problema

económicamente usted sabe que funcionaba que había partida presupuestaria con abere

que no interesa se menosprecia y más si el acuerdo entre los grupos que sustentamos al gobierno que luego no quieren participar y dicen que no es

pues luego no hablen de voluntad porque la voluntad está clara y luego también es curioso que la señora etxebarria nos acuse de que es

que dice siempre lo mismo cuando ustedes en el punto dos instan al gobierno vasco a que realice lo que ya están realizando las diputaciones forales menos contenido que eso pues yo creo que no hay y luego

que tampoco no iban a votar la nuestra por supuesto dijese lo que dijese y la del pp le faltan cosas mire sabe a qué iniciativa le faltan cosas y voluntad a la suya a la que no han presentado porque cuando de agricultura y ganadería se trata es que no presentan absolutamente nada y bueno y si se trata de desconocimiento pues mire es hasta justificable

no solo no es justificable sino que es que además es insultante así que yo

bai bueno a ver en primer lugar

nuestra proposición inicial es decir lo que pretendíamos hacer en un primer inicio era apoyar la iniciativa del partido popular porque de hecho iba en línea como se ha mencionado con lo que nuestra formación política ha apoyado ya

íbamos a hacer mención respecto a ciertas cuestiones que nos parecía que faltaban como

en su redacción original y en ese sentido no ha habido proposición de enmienda lo que sí nos ha sorprendido es que finalmente lo que seguro no íbamos a apoyar que era la enmienda planteada por los partidos que sostienen o los grupos

a sostener la proposición ahora reconvertida en propuesta del partido popular también porque creemos que ya digo no atiende a la razón original por la que se ha

la propuesta que era para atender a una situación muy concreta derivada por el covid y se ha derivado en algo que se dice que va mucho más allá que es una problemática estructural que bien compartimos pero este no es el propósito de la cuestión aquí se hablaba de apoyo a contrataciones temporales con motivo de sustitución a razón del covid y

fundamental plantear líneas directas de apoyo y a su vez también hacerlo en coordinación que así figura en la enmienda planteada por eh bildu en este caso también hacerlo en coordinación con los sectores implicados que tampoco figura en la planteada por parte de los partidos que sostienen al gobierno vasco y a su vez también establecer la bolsa de empleo y en este sentido nosotros

que va a ser la de no apoyar la propuesta planteada por los grupos que sostienen al gobierno y en este caso también con el
apoyo o aquiescencia del partido popular y sí a la enmienda planteada a la totalidad eskerrik asko soto jauna eztabaida amaituta